otra vez aquí otra vez trebiñu y otra vez pidiendo que hagamos los deberes

otra vez esperando que los políticos y las políticas nos pongamos las pilas y demos respuestas a ver si esta es la definitiva estamos ante una oportunidad histórica como parece que han sido el resto para tomar medidas aunque la historia nos demuestra que

de forma efectiva a esta reivindicación actual

de forma premeditada o tal vez está muy bien estudiada vamos a ser valientes vamos a escuchar lo que nos piden desde trebiñu y vamos a tomar medidas

como a las que viven en araba no es nada del otro mundo no queremos personas de segunda en este territorio para euskal herria bildu trebiñu es la octava cuadrilla de araba

tiene que serlo de hecho y tiene que serlo de derecho hay que pasar a la práctica y en eso tenemos que exigir responsabilidades yo creo que más a unos que a otros pero a todos los grupos de esta cámara

los ciudadanos y ciudadanas que viven en treviño sufren dependencia administrativa de burgos sufren

pérdida de calidad de vida y convierte el día a día en algo insostenible

en el enclave han pasado veinticinco años desde que el senado

recomendó dar una respuesta a treviño veinticinco años ya que suponen una generación

que se han ido a la basura veinticinco años que no han servido para dar una solución a treviño a quienes viven y sufren las consecuencias de vivir en el centro de araba sí es verdad pero que tienen que dar cuentas

hace quince días traje aquí trajimos la interpelación en la que preguntábamos por una declaración institucional

preguntábamos concretamente la posición del gobierno vasco en relación a esta declaración y una explicación del sentido de su voto pero sobre todo nos interesaba conocer la posición del gobierno respecto a treviño preguntábamos también cómo iban a garantizar los derechos de las personas de treviño y los pasos que iban a seguir dando la respuesta del gobierno

fue una respuesta bastante autocomplaciente por decir algo suave y fue una respuesta donde quedó bien claro que treviño desde luego no está en las prioridades de este gobierno

quedó claro también que se han ido poniendo parches durante muchos años pero que ha faltado valentía política

y diversas negociaciones que hay y que se dan en madrid la respuesta fue que ya se han dado muchos pasos bueno que se ha trabajado mucho efectivamente que se ha debatido mucho efectivamente y que siguen en ello sinceramente lo dije entonces lo vuelvo a repetir hoy fue un fraude de respuesta y una decepción pero nada nuevo porque llevamos veinticinco años decepción tras decepción desde nuestro grupo vemos dejación y vemos más de lo mismo

supone tantos prejuicios lo acabamos de ver y sufrir en estos últimos momentos iba a decir estas últimas horas

vasca desde la parte alavesa sino también desde las personas que viven en treviño que la ciudadanía

es algo muy sencillo y muy lógico desde luego

y digo esto porque mientras la diputación foral de araba en este caso mueve algo pero mueve algo para no mover nada una vez más pero no lo digo yo además

en un monasterio en un acto súper sobreactuado delante de un montón de banderas y llenos de buenismo fue un acto bastante bueno fotográfico fotográficamente quedó muy bien

convenios puntuales convenios insuficientes y convenios escasos

que no son novedosos muy al contrario son acuerdos previos que se venden como una novedad que es diferente

año y pico el diputado general de araba el señor gonzález decía textualmente tenemos que hacer compatible

a su situación con mejorar la calidad de vida a sus ciudadanos y para ello firmaremos convenios de colaboración ha pasado un año y dos meses han firmado los convenios que ya se estaban haciendo discúlpeme si me suena a que esto es vender humo de los catorce convenios pendientes que hay realmente los que se van a cumplir van a ser siete esto es lo que hay y esto es lo que tenemos encima de la mesa

unos convenios que dejan fuera temas absolutamente estructurales estamos hablando de sanidad de educación de agricultura de agua de saneamiento de transporte

no interesa políticamente no interesa porque es una zona rural porque tiene pocos habitantes porque no tiene votos vamos a ser claros

seamos valientes una vez por todas escribamos lo que estamos pensando y lo que de cara a la galería hacemos y décimos

así que la lectura es clara se negocian los convenios para dar servicios pero en temas de territorialidad no se avanza no se quiere avanzar nadie pone por delante la voluntad de las personas

y tampoco se les pregunta cómo y con quien quieren vivir es algo muy sencillo se siguen poniendo parches

y aburridas el pasado mes de mayo el ayuntamiento cansado también como nosotros

por cierto señor erkoreka no en todas las administraciones y en las instituciones

con mayoría aho batez no me sale en castellano unanimidad muy bien

exclusivamente y ahí fue se pidió un convenio global definitivo y una hoja de ruta que culminase con la decisión libre y democrática de los treviñeses salió adelante efectivamente pero hubo votos en contra

del partido popular y de la alcaldesa pero salió adelante con el resto de partidos bueno una declaración donde queda clara que la voluntad política y el posicionamiento político pues

por un lado negocian con el partido popular los presupuestos que por supuesto treviño ni aparece y por el otro lado a la semana siguiente se aprueba la moción de censura para hacer presidente

en la que treviño por supuesto tampoco aparece oportunidades perdidas de nuevo el ayuntamiento de treviño toma la iniciativa una vez más

tras varios portazos porque no se da el primer portazo que se llevan después de veinticinco años

que acaban de solicitar me callo porque no puedo hablar isiltasuna mesedez

de los alcaldes de los dos ayuntamientos de treviño en el senado y efectivamente es así pero para qué si somos incapaces de llegar aquí a un acuerdo efectivamente lejos de alegrarme

han visto o hemos visto tantos problemas de comas de puntos y de derecho a decidir de nada va a servir una comparecencia en el senado más que de pura y dura propaganda hagamos política en mayúsculas yo creo que eso es nuestra labor aquí es fundamental hacer la política en mayúsculas seamos valientes yo no creo que pida nada nuevo

necesidad de convenios de acuerdos y de seguir dando vueltas en la misma rotonda después de muchos años de inacción perdóneme se han dado paso pero bueno no se han visto ya es hora de defender de verdad a treviño de ahí que

esperemos que no les den un portazo una vez más y que se aproveche la oportunidad histórica

para avanzar de verdad en el derecho a decidir y para poner encima de la mesa a las personas que viven

egunon guztioi gracias señora presidenta comenzamos el pleno de hoy debatiendo una moción que trae a este pleno euskal herria bildu relativa a los pasos a dar para la integración de treviño en araba el contencioso de treviño parte de la demanda ciudadana que pide en el condado de treviño y la puebla de arganzón que son los dos municipios del enclave de treviño para integrarse en el territorio histórico de álava

aún estemos asistiendo a debates de esta naturaleza que son producto del anacronismo administrativo y del bloqueo institucional mientras hay

en el acceso a los servicios públicos no ha existido sin embargo hasta ahora un referéndum completo y aceptado por todas básicamente

porque entienden las ciudadanas de estos municipios al igual que nosotras

los servicios y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del enclave es cierto que se ha firmado el acuerdo marco de colaboración entre la diputación foral de álava y la diputación

del veintinueve de marzo en el que se garantizan la prestación de una serie de servicios en materias como servicios social bomberos euskera infraestructuras

invernal o transportes es un convenio

ampliables a otros dos y que además requiere del compromiso por parte de la junta de castilla y león con competencias fundamentales como son la atención sanitaria

es evidente que no son una solución definitiva y que dejan el futuro de treviño a merced de los deseos de las instituciones en cada momento hace un año

firmaron una moción pidiendo integrarse total y legalmente en el territorio histórico de álava pero que sean los políticos y las instituciones con competencias quienes busquemos la fórmula legal más adecuada desde la aprobación

hasta una ley orgánica exclusiva para este enclave han sido numerosas las ocasiones en que en el parlamento vasco se han abordado la situación de treviño pero la realidad es ahora distinta a las anteriores ya que hace algo más de dos meses las diputaciones de burgo y araba suscribieron un acuerdo histórico

a los vecinos de este enclave después de dos décadas largas de conflictos administrativos así han sellado su cooperación en materias como la protección civil

la integración y atención social a personas mayores discapacitadas y dependientes la lucha contra la violencia de género o el impulso de la promoción de actividades culturales y educativas y de normalización del euskera sin embargo

y que es necesario facilitar e impulsar las medidas que completen la integración total de ambos municipios en araba es hora de dar una solución definitiva

a lo que las propias treviñesas y treviñeses piden para mejorar sus vidas y su día tan sencillo como eso y son ya casi ciento treinta intervenciones realizadas en las instituciones alavesas con el tema de treviño

realizadas en esta cámara en el congreso de los diputados y en el senado y no voy a hacer el recuento de las declaraciones institucionales que se han hecho en apoyo a las ciudadanas de ambos municipios y aún así seguimos en esta situación no voy a hacer

se ha dado con la puerta en las narices a la población de treviño estamos ante un problema normativo y administrativo pero sobre todo político empezando por la voluntad

desde hace siglos empezó cuando se empezó a conformar la hermandad de álava

y los señores de arganzón y treviño se negaron a integrarse en la misma

pasar al entramado administrativo alavés y cuatrocientos años después seguimos en las mismas tampoco nos sirve de mucho seguir hablando de los intentos frustrados

para estudiar la situación de los enclaves con dos recomendaciones una ley orgánica que resolviera la situación de los numerosos enclaves y de diferente naturaleza y un desbloqueo de la situación para que puedan aplicarse los estatutos de gernika y castilla y león y en dos mil once constituyó la comisión pero no hubo consenso porque las instituciones de castilla y león bloquearon el avance hacia una situación definitiva

la proposición de ley de incorporación de treviño al territorio histórico de araba presentada por el parlamento vasco resultó rechazada y ahora en qué situación estamos en una situación administrativa de transitoriedad precariedad e inseguridad jurídica para treviño en que la alternativa racional por transferir la titularidad del enclave a las instituciones de araba y de euskadi en que treviño lleva demasiado tiempo sufriendo las consecuencias de esta sinrazón

y finalmente en que la solución es exclusivamente política y que los partidos que estamos hoy aquí y tenemos representación en las cortes de castilla y león

tenemos que hacer los deberes con nuestros grupos políticos por ello desde elkarrekin podemos hemos presentado una enmienda

presentada por eh bildu en la que solicitábamos que el parlamento vasco se comprometa a estudiar en el marco de la ponencia de autogobierno nuevas soluciones y alternativas para el desbloqueo de la situación en la que se encuentra el enclave de treviño

a que en el marco de sus competencias escuchen y respeten la voluntad de las personas que habitan en el condado de treviño

y que faciliten la incorporación de estos municipios a araba y además que el parlamento vasco

a convocar un referéndum legal y con garantías para que la ciudadanía de los ayuntamientos de treviño y la puebla de arganzón pueda manifestar de forma inequívoca sobre la incorporación a araba además nuestro grupo tanto en las cortes de castilla y león se ha reunido con representantes de los ayuntamientos de treviño como los propios senadores de unidos podemos

y han trabajado en el congreso para acabar de una vez por todas con este anacronismo que tan perjudicial está resultando para quienes de facto son la octava cuadrilla

en elkarrekin podemos queremos y creemos que la situación de treviño tiene que alcanzar una situación una solución definitiva que sabemos pasa por una ley orgánica en el congreso que cambie los límites territoriales posibilitando que treviño

no podemos ni debemos ser espectadores de lo que va pasando o mejor dicho de lo que no está pasando nos piden

jurídico administrativo y eso es lo que tenemos que hacer creo que las cartas están sobre la mesa que todos aquí y en treviño

y sabemos qué es en el congreso de los diputados donde se tiene que solucionar este asunto por nuestra parte que estamos en contacto permanente con las compañeras del grupo de unidos podemos y que son sensibles a las reivindicaciones centenarias de treviño solamente queda unirse

buenos días gracias presidenta lehendakari consejera consejeros

bien volvemos a hablar de treviño en esta cámara y en esta legislatura y desde luego lo que tiene que decir este parlamentario

y el grupo al que representa es que mi grupo está a favor

lo ha estado y desde luego eso es lo que nosotros como grupo parlamentario pues queremos y como partido también

además la realidad de treviño está íntimamente ligada y relacionada en múltiples aspectos con álava con vitoria

reconocen y es verdad y lo reconocen y por eso cada día quizá aunque sean pequeños o para algunos imperceptibles pero bueno hay pasos

hay una razón ahí hay una razón territorial y hay una razón con la que hay que trabajar nosotros vamos a valorar la realidad institucional también lo tenemos que hacerlo es complicada forma parte de dos entes institucionales diferentes

pero vamos a valorar vamos a valorar la colaboración existente queremos hacerlo en la enmienda de totalidad que hemos presentado

en lo institucional qué sería bueno

en el senado que es la cámara territorial sería una buena noticia pero depende de las iniciativas o de las cosas que los grupos hagan en aquella cámara nosotros entendemos que la negociación en las cortes sería la solución pero en cualquier caso

a la representante de bildu se ve que no le vale nada y critica además lo que son avances y lo que es una progresión en sintonía entre las administraciones y eso también hay que valorarlo quizá últimamente hemos visto una sintonía que antes no existía bueno pues nosotros vamos a valorar lo que hay

lo que hay queremos hablar en positivo valorando esos avances desde el optimismo

arroyabe se coloca nosotros vamos a tratar de verlo desde el optimismo y por eso nosotros sí que queremos pensar y sí nos gustaría que el parlamento vasco

que es en el marco institucional de ese diálogo de esa sintonía del respeto estatutario de la colaboración

donde se debe instalar el ámbito de actuación del conjunto de las administraciones autonómicas forales y locales en lo

por ello valora los avances que en ese sentido se han realizado con la reciente firma de los siete convenios ustedes se han referido entre la diputación de burgos y la diputación foral de álava

ambas instituciones en abril de dos mil diecisiete y aprobado por las juntas generales de álava este es

es el mejor camino en la actualidad por el que se está avanzando independientemente de que se puedan llegar a otros en la negociación política en otros ámbitos en el senado en el congreso de los diputados en las cortes en relación con esos avances o en la propia negociación entre las propias administraciones en la administración vasca y en la administración de castilla y león en relación con

esa sintonía de cara a la definitiva integración de treviño en álava está claro que hemos valorado nosotros el acuerdo marco suscrito entre las administraciones el año pasado en dos mil diecisiete porque ahí se dicen cosas se dicen cosas en relación con

comprendido en el territorio de álava concurre una singular razón territorial

en la que se instala este documento este acuerdo marco pero también

en documentos firmados por las dos administraciones esa singular razón territorial y además ese acuerdo marco indica que

en su caso modificados o en su caso alterados por otro tipo de legislación y entendemos que

esta andadura en la sintonía de los siete convenios en la

que se aprobó en las juntas generales de álava en relación con el acuerdo marco de colaboración entre álava y burgos es el camino efectivamente querríamos algunas cosas más pero bueno si se promueven hoy ojalá

como son las instituciones centrales el congreso o el senado y ojalá se den los pasos

es esa es que ojalá se pueda alcanzar pero bueno en cualquier caso

esa sintonía que se ha materializado una vez más en seguir progresando seguramente

le será insuficiente pero esa labor de los siete convenios en relación con la cooperación en labores de protección civil atención a emergencias integración y atención a personas mayores dependientes

menores de equipamientos e infraestructuras así como de bienes artísticos calificados o protegidos promovidos por los ayuntamientos

con la juventud bueno pues con esa finalidad de mejorar de forma sistemática las relaciones de colaboración para la prestación de servicios en el enclave

no es el paso definitivo desde luego el que todos queremos en esta cámara pero es un paso más que hay que valorar en la sintonía de lo que yo le decía al principio en la sintonía de que

por primera vez en un texto firmado también por las autoridades castellano leonesas se habla de que concurre una razón territorial singular

de estas características nosotros entendemos que ese es el paso es el paso

forjando esas colaboraciones esas sintonías

esa iniciativa que valora lo que valora lo que se ha alcanzado ojalá en otros ámbitos donde se puedan decidir estas cuestiones este no es el caso del parlamento vasco

para la integración de treviño en álava muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

compartimos que treviño debe de formar parta de

lo compartimos por unanimidad en esta cámara se ha compartido así ya en fechas anteriores lo que no compartimos es que al respecto de este asunto solamente haya una legitimidad la de los alaveses y que los pasos que se han dado no hayan sido positivos como trataré de demostrar

efectivamente sobre este asunto tienen legitimidad los alaveses tenemos legitimidad los vascos

leoneses y también tiene legitimidad el conjunto de los representantes de españa en las cortes generales porque en definitiva su solución necesita de una ley orgánica que resuelva una desanexión y una anexión en su día compartimos también hace ya muchos años algunas décadas

la ponencia de enclaves de el senado hiciera aquella radiografía de los enclaves que en españa estaban precisando de una solución

tuvo un interés tuvo una razón de ser y también creemos que ya ese no es el camino porque no se resuelve un problema planteando sobre la mesa veintidós

los problemas de uno a uno siempre la historia de la política enseña que es la mejor forma de resolver los problemas de uno a uno a nosotros nos parece que es un avance significativo el que una comunicación que estaba rota hace muy pocos años entre

haya vuelto a encontrar un camino de entendimiento suscribiendo esos convenios y abriendo la puerta a poder suscribir más convenios que le den una atención por proximidad a la ciudadanía de treviño eso nos parece un avance

el avance más significativo que se ha producido después de haberse dado la unanimidad en esta cámara en reiteradas ocasiones para reclamar que treviño sea álava

el día dieciocho de noviembre de dos mil catorce llevamos una proposición de ley orgánica

que salió de este parlamento que no tuvo ningún voto en contra aunque hubo la abstención de dos grupos pero que no tuvo ningún voto en contra y que además tuvo el arrope del conjunto de los grupos cuando se sustanció aquello en aquella tarde en el congreso de los diputados allí ya se dio un primer avance

y es que si no hubiera habido legitimidad para defender esa proposición de ley orgánica el congreso de los diputados en este caso la mesa

las iniciativas hubiera tenido la capacidad de haber denegado la tramitación sin embargo la tramitación se hizo la mesa consideró que estaba adecuada

iniciativa y por lo tanto en aquella ocasión lo que se sustanciaba era la toma en consideración es cierto que aquella toma en consideración no prosperó

uno de los argumentos decía que tenía que haber previamente una colaboración un encuentro un diálogo entre euskadi

diálogo encuentro que se ha intentado en muchas ocasiones y que las instituciones de castilla y león siempre han estado a ellas por lo tanto volver a hacer la apelación en aquel momento

no se tomaba en consideración era un argumento débil que sigue existiendo y que habrá que seguir intentándolo pero en cualquier caso si nosotros dábamos el salto de la proposición de ley orgánica es porque el diálogo entre ambas administraciones que hubiera sido el camino más correcto y más directo estaba bloqueado como

no dejamos en el interés de que se recupere ese diálogo

se plantea ese camino el camino de formar un grupo un grupo institucional en este caso liderado por el gobierno vasco se traslada de este parlamento al gobierno para que vuelvan a poder plantear una nueva proposición de ley orgánica que resuelva definitivamente este asunto el segundo argumento que se utilizó entonces es que había que hacer todo esto dentro de la ley y efectivamente estábamos dentro de la ley cuando nos presentábamos

cuando habíamos presentado una proposición de ley orgánica y cuando había sido aceptada a trámite por lo tanto este es el camino y además yo creo que este es un camino que dibuja una ejemplaridad de las instituciones del enclave de treviño de los ayuntamientos de sus representantes porque desde hace muchos años vienen insistiendo de forma reiterada y con acierto

institucional porque sea la vía del diálogo porque sea la vía de la legalidad la que resuelva este asunto nosotros no tuvimos ninguna duda el grupo socialista no tuvo ninguna duda en apoyar esa iniciativa se nos planteó en esta cámara y por eso precisamente es por lo que surgió ese acuerdo mayoritario sin ningún voto en contra para que se pudiera tramitar de esa manera creemos que ese es el camino creemos que los precedentes avalan a insistir en esa situación

es difícil porque efectivamente se contraponen legitimidades distintas intereses distintos y ritmos en la política diferentes todos los grupos políticos obviamente no tenemos ni el mismo ritmo político ni la misma forma de interpretar

y sin embargo también defendemos con valentía y con claridad lo que son nuestras posiciones políticas hay quien piensa que con la simple expresión de los ciudadanos de treviño con la única legitimidad de los ciudadanos de treviño con la manifestación

ciudadanos de treviño esto ya está resuelto porque los demás lo único que tienen que hacer es respetar lo que estos ciudadanos planteen y lo que las

de acuerdo con ello les podamos acompañar no es así lo he dicho en el inicio de la intervención hay distintas legitimidades el camino por lo tanto hay que recorrerlo de forma colaborativa hay que hacerlo convenciendo unos y a otros hay que hacerlo buscando que nadie se sienta mal y que nadie se sienta perjudicado y yo creo que al final lo conseguiremos pero lo conseguiremos si no erramos en el camino

si no rompemos las mayorías que se han creado anteriormente si no desandamos el camino andado me parece un error político querer provocar que por encima de ese camino de proposición

orgánica por encima de esa posibilidad de hacerlo de forma legítima e institucionalmente se quiera hacer solamente

me parece que esto debilita la posición que ya había alcanzado este parlamento

espero que la enmienda que hemos presentado el grupo nacionalista y el grupo socialista pueda servir para que cuente con el apoyo con el acuerdo con la compresión de los demás y para que busquemos una vía unitaria una vía de integración una vía de entendimiento una vía unilateral que siempre será un fracaso por lo tanto no es valiente plantear el hacer las cosas de parte no es valiente plantear el derecho a decidir cuando no existe ese derecho a decidir cuando ese derecho a decidir es simplemente

no es valiente engañar a los ciudadanos diciendo que solamente con la llamada al derecho a decidir los problemas se resuelven en un estado de derecho es
un planteamiento tramposo es un planteamiento inconsistente y una vez más se va a demostrar muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

historikora batzea ahalbidetuz el parlamento vasco insta al gobierno vasco a dar respuesta a las legítimas aspiraciones de los ciudadanas y ciudadanos de treviño mediante la creación de un grupo de trabajo con todas las instituciones implicadas que lleve a cabo una propuesta resolución que incluya una ley orgánica para su aprobación en cortes generales

en el territorio histórico de araba antes de continuar

nuestro grupo nuestro partido evidentemente confían piensan y trabajan para que

tiempo posible treviño sea la octava cuadrilla de araba

en parte de acuerdo con el fondo de la moción originaria

pero también en un fondo de un mundo utópico estamos en el siglo veintiuno y la decisión exclusiva

no es suficiente para condicionar el que ese enclave pertenezca a una comunidad autónoma o a otra quizás en un mundo de utopía fuera posible pero todos sabemos que en este mundo real en este momento eso es imposible que

ni exclusivo ni la condición única como decía la moción de bildu en el asunto de treviño tenemos ya no se puede hablar ni de unilateralidad ni de bilateralidad habría que hablar quizás de pentalateralidad por qué porque hay cinco organismos implicados

la diputación foral de álava la junta de castilla león el gobierno vasco y evidentemente las cortes generales de madrid con lo cual la cosa se complica y no se puede

puede ser la principal condición para el arranque de este proceso pero no es ni la condición única ni la condición exclusiva como decía la moción

y supresión de las provincias ya lo dejaba claro la competencia estatal para modificar el territorio provincial mediante ley orgánica

que las previsiones estatutarias se puedan regular de forma específica la modificación del territorio de una provincia

las modificaciones provinciales la decisión en estos casos solo puede caer en el estado ya que en caso contrario la resistencia de la comunidad autónoma cedente de una parte de su territorio o de la adquiriente

no condiciona las competencias de las cortes generales para mediante ley orgánica decidir letradamente sobre la cuestión en todo caso habría que entender que la competencia estatal

se produce como consecuencia de una iniciativa de la población afectada

a la misma dictando la correspondiente ley orgánica

evidentemente no va muy rápido pero quizá sea

la capacidad de resolución no la tenemos solo en euskadi sino que también depende

van a comparecer en el senado yo no estoy de acuerdo

que evidentemente se puede localizar en la alta política y el nivel de la diputación foral de álava que lo que hace es atender más prácticas más habituales y más útiles de los habitantes de treviño yo voy a leer las trece materias que alguien ha citado pero no las trece para que veamos cómo la preocupación de la diputación foral de álava evidentemente también está presente

pero están en vías de solución de esta forma veremos como también la preocupación de la diputación foral de álava es de la vida diaria de la práctica de los habitantes de treviño

protocolos y coordinación en la lucha contra la violencia de género políticas públicas en materia de igualdad políticas públicas en materia de juventud protección civil y atención de emergencias en particular en materia de prevención y extinción de incendios y salvamentos infraestructuras de comunicación y transportes

proyectos de conservación mantenimiento restauración de bienes artísticos calificados o protegidos con sistemas de protección cultural proyecto de protección del medio ambiente y de espacios singulares recogida y gestión de residuos

como el apoyo desarrollo e impulso a las personas y a los proyectos que se ubiquen en el medio rural colaboración en la gestión de la recaudación municipal

y por último el punto número trece promoción de actividades culturales educativas aprendizaje y normalización del euskera entonces yo creo que estamos trabajando en una doble vía por una parte

intentar armonizar la opinión de estos cinco organismos diputación de burgos diputación foral de álava

gobierno vasco y las cortes generales pero no estamos olvidando creo yo a los habitantes de treviño y a sus necesidades

creo que esta doble forma de trabajar es la única posible la diputación a su nivel se ocupa de facilitar los servicios que tienen los treviñeses a quince kilómetros en gasteiz en lugar de a cien kilómetros en burgos

con esta enmienda que hemos hecho se deberá de preocupar de coordinar a los cinco organismos para que se pueda presentar una ley orgánica en madrid entonces yo acabo como he empezado estaríamos de acuerdo en el fondo de la originaria de bildu pero nos parece que es vender utopías es decir creo que no se puede decir en la época en la que estamos que la opinión de los treviñeses es la condición única e indispensable para

hay cinco organismos hay unas competencias e insisto no hablamos ya de bilateralidad tenemos

y mientras tanto yo creo que se está cumpliendo con los dos aspectos con intentar

y también con intentar que día a día la vida de los treviñeses sea una vida mucho más práctica mucho más fácil y que dependa en cuanto a los servicios

el parlamento vasco insta al gobierno de la comunidad autónoma vasca a la comunidad de castilla y león y al gobierno del estado español a que acepten la voluntad

del enclave de treviño esta debería ser por tanto la única condición para la integración de los municipios de treviño

creo que queda bien claro al partido popular le pido lo que ponen en su moción algo tan sencillo pedirle diálogo respeto colaboración nosotros también estamos dispuestos para eso nada que no ponga en su enmienda si de verdad están a favor de que treviño no sea araba tienen una oportunidad de oro a partir del día veintiséis en el senado

para ser positivos y para seguir dando pasos al partido socialista tampoco nada nuevo responsabilidad tan sencillo que hagan lo mismo aquí que en madrid

les pedimos eso acuerdo apoyo y comprensión estando de acuerdo si están de acuerdo en todo lo que pone pero no se han dado pasos pero cuándo se va a conseguir

creo que no son veinticinco solamente son veinticinco desde que el senado lo aprobó son cuatrocientos desde que el condado de treviño existe ahí en medio de araba la política real está para dar respuestas rápidas y efectivas a elkarrekin podemos darle las gracias por los intentos de negociación iba a decir de esta noche porque así ha sido

de negociar y por su valentía política también porque yo creo que en los puntos que estamos dispuestos

dar pasos efectivos y yo de verdad desde nuestro grupo os lo agradecemos enormemente y al partido nacionalista vasco bueno

no es que me sorprenda es que sinceramente me duele estamos hablando de dar de prestar servicios pero es porque no estamos dando pasos y estamos mirando

para qué estamos dando servicios para no mirar al tema territorial que nos evitaría seguir dando servicios no harían falta convenios no haría falta nada sería la octava cuadrilla de derecho que es lo que estamos pidiendo por favor no vendan humo no estamos hablando de octava cuadrilla para limpiar las carreteras de la nieve

están a favor en el fondo de la moción y entonces qué impide firmarla estamos a favor del fondo de la moción y somos incapaces de firmarla

si no les importa la opinión de las personas que viven en treviño solamente son dos problemas por un lado díganlo

díganlo cuando van a treviño a pedir votos díganlo no es lo principal vuestra opinión bueno pues díganselo y no sigan mareando

con negociaciones mientras otros debaten deciden hablan pero quién ha preguntado a la ciudadanía de treviño pero si es que son los primeros que tendrán que decir qué

no es que esto vaya lento no es que este proceso vaya lento es que este proceso no va es que este proceso no adelanta estamos hablando

que no que nos están engañando o sea que no puede ser haciendo convenios que ya se estaban cumpliendo eso es poner encima del papel algo que se estaba haciendo para decir que estamos haciendo por favor por favor

no solamente esta institución todas tienen obligación de escuchar cosa que con treviño no se hace de facilitar creo que tampoco se hace de respetar

y de materializar muchísimo menos tienen oportunidades en el senado el día veintiséis efectivamente en el congreso efectivamente muévanse el único límite

es algo tan sencillo por nuestra parte estaremos dispuestos a colaborar a negociar

a andar no a quedarnos sin hacer nada eskerrik asko

gracias presidenta señorías lehendakari consejera consejero buenos días de nuevo

un acuerdo unánime en relación con una proposición no de ley relativa a la situación museística en euskadi desde luego

está comisión tuvo la oportunidad de realizar una visita

y desde luego ahí se estimularon alguna serie de iniciativas hubo también una interpelación realizada al señor consejero de cultura en relación con ese museo

lo bueno no fue haber hecho una moción en relación con esa cuestión sino entender

una reflexión general sobre la situación museística partiendo del tema

con dificultades y limitaciones pero entender que podíamos buscar algún acuerdo en ese sentido la visita

dio con algunas claves en relación con este tipo de museos

museos etnográficos en el país vasco todos con alta importancia son museos

en otros casos también son museos con una dimensión humana muy interesante son muy interesantes son museos a la estatura

muchos de ellos interactúan como centro de arte que son pero centro de cultura que son de historia que son interactúan con la ciudadanía interactúan con los estudiantes tienen elementos que hacen que la ciudadanía

además hay una colaboración ciudadana en muchos casos

voluntariamente desinteresadamente en que funcionen ese tipo de iniciativas culturales en el caso

de esa colaboración ciudadana y de esa dinamización cultural asociación etnográfica artea desde hace tantos años gestionando con voluntarios con personas altruistas ese museo en concreto pero

además estos museos se integran en el entorno no necesariamente de ciudad

de los habitantes de determinadas comarcas del núcleo urbano rural al que pertenecen del baserri de los negocios con unas características

de la colaboración popular de la cooperación popular de la aportación y de la donación popular

donde además de lo que se expone hay una realidad cultural activa además eso lo que comentaba antes no centrarse solamente en las ciudades que también hay

en otros ámbitos como el ámbito rural los pueblos las comarcas las cuadrillas bien efectivamente como también se dijo en la interpelación hablábamos en aquella del museo etnográfico de artziniega pero hay más museos hay más museos etnográficos

que merecen nuestra atención el consejero de cultura ya hizo repaso de la cuestión también tenemos el informe estadístico dos mil dieciséis

que en ese camino hemos querido trabajar en relación con el acuerdo y con la enmienda de transacción a la que hemos llegado yo quiero agradecer

esta cuestión que ha sido fácil

a este acuerdo en relación con lo que podemos hacer y por eso mismo son seis los puntos que hemos acordado

un punto de reconocimiento de la labor que como promotores de la cultura realizan los museos en euskadi en general y en particular los museos etnográficos hemos llegado a un segundo punto

cauces de colaboración ya existentes con las instituciones forales y locales para el mantenimiento y sostenibilidad de los museos colecciones e iniciativas culturales reguladas por la ley

o que requieran de nuevos apoyos institucionales respetando el marco competencial existente en euskadi es un elemento fundamental algunas de estas realidades

encontrarlas y desde luego la colaboración institucional es básica asimismo se insta también al gobierno vasco a que a través del observatorio vasco de la cultura del consejo asesor

entidades y ámbitos que funcionan en esta realidad cultural revise el informe sobre museos y colecciones de euskadi proponiendo en su caso nuevas medidas de apoyo dentro de la convocatoria de subvenciones

también que el parlamento vasco inste al departamento de cultura del gobierno vasco un elemento también importante a impulsar la creación de red de museos etnográficos que permita trabajar problemáticas de manera conjunta y establecer colaboraciones

de lectura pública puede haber perfectamente otro tipo de redes como los archivos etcétera yo creo que en este asunto también las nuevas fórmulas de gestión también hace que

que permita trabajar esas problemáticas el parlamento vasco reconoce la labor de emsime como catálogo colectivo en red

de euskadi e insta al gobierno vasco a que realice una mayor difusión de dicha herramienta con el fin de que todos los museos etnográficos vascos puedan incluir en la misma sus fondos recordamos que emsime es un sistema de gestión documental que reúne información e imágenes de los bienes culturales

y privada y ahí donde se puede consultar información sobre esos museos integrados en el sistema así como información sobre

que realizan por eso es bueno que se valore ese trabajo ese catálogo pero también que se ponga en difusión y por último teniendo en cuenta el carácter diverso de los museos

basado en la museología moderna y las gestiones culturales e innovadoras

de un grupo enmendante en relación con que claro que cada día se avanza rápidamente en lo que son las técnicas

la innovación por eso es bueno que se pueda estudiar se pueda analizar

departamento desde luego con sus expertos en el observatorio vasco de la cultura

en los ámbitos que dependen de las instituciones forales que también tienen mucho que decir en ese sentido por eso nos felicitamos por el acuerdo entendemos que ponemos a trabajar también al gobierno en una cuestión en la que desde luego

muy organizada muy concreta puntual y desde luego damos y queremos que todo esto sirva para fundamentalmente para que todas esas realidades culturales

determinados esfuerzos y apoyos suplementarios pues los puedan conseguir esperemos que eso sea así porque es bueno para todos es bueno para la cultura para la historia

en definitiva pues para todos nosotros así que muchas gracias

gracias de nuevo señora presidenta y buenos días otra vez a todas las parlamentarias nos toca

en torno a una iniciativa que como bien ha explicado el señor barrio que me ha precedido ha presentado el grupo popular relativa a la elaboración de un informe por parte del gobierno vasco sobre la situación museística en euskadi

el mapa museístico en nuestra comunidad está compuesto

y entre ellos podemos encontrarnos desde seis de carácter etnográfico hasta otros dedicados a la sidra a la miel las mariposas incluso uno de la ertzaintza o los más visitados como pueden ser

el museo de san telmo los museos son espacios gracias los museos como decía son espacios de creación educación y aprendizaje han de ser vivos y estar en constante diálogo con la sociedad y con los diferentes agentes del sector así como

que los visitan y que los disfrutan además desde elkarrekin podemos entendemos que la red museística de euskadi necesita

en torno a ellos lo hagan en condiciones de trabajo dignas y acordes a los convenios firmados esta iniciativa como bien ha explicado

y nosotras valoramos muy positivamente todas las iniciativas y medidas que sirvan para fortalecer y dotar de recursos

por ello nos parece importante reconocer la labor que como promotores de la cultura realizan los diversos museos en euskadi haciendo especial hincapié en la labor que realizan los museos etnográficos

desde mi grupo político creemos que es fundamental la coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles administrativos así

con los que cuenta el departamento de cultura y política lingüística del gobierno vasco en esta línea la realización de un estudio de la situación museística de euskadi que realice una fotografía exacta y que señale y centros que necesitan ayuda específica para su mantenimiento y sostenibilidad como primer paso es prioritario en el ámbito de la cultura en euskadi

asesor de museos han de ser los encargados de acometer esta tarea y revisar el informe sobre museos y colecciones de euskadi elaborado cada dos años junto con el centro de museos de la dirección del patrimonio cultural del departamento de cultura

ha de publicarse como se indica en la enmienda que hemos consensuado antes de que finalice el año dos mil diecinueve proponiendo en su caso nuevas medidas de apoyo dentro de la convocatoria de subvenciones a museos y colecciones sin embargo aunque estamos de acuerdo con este punto y por ello hemos firmado la propuesta tenemos que señalar desde elkarrekin podemos que dicho informe

y se hizo en el dos mil dieciséis por lo tanto tendría que haberse hecho otro en el dos mil dieciocho y vamos y estamos ahora mismo alargando

establecidos además los órganos a los que hacemos referencia el consejo asesor de museos y el observatorio vasco de la cultura no se reúnen más que una vez al año y esta situación nos preocupa creemos que este puede ser un buen punto de partida para reactivar una y unas políticas y unas medidas que se tienen que tomar en el ámbito de la cultura partiendo de dos órganos que a día de hoy no tienen la actividad o no tienen tanta actividad como nos gustaría además

se trata de un informe descriptivo que aporta cifras del número de museos y de colecciones inscritas en el registro del gobierno vasco pero en ningún caso tiene por objeto evidenciar la falta de apoyo institucional que algunos museos demandan

que en este último empujón que espero se le dé desde esta partiendo de esta iniciativa se le dé otro enfoque y nos gustaría

orientar el estudio y el informe hacia un estudio de la infrafinanciación o a la dotación de los museos por parte

por lo tanto este informe tenemos ahora la oportunidad de que se plantee en otros términos y que refleje una realidad que se pudo comprobar hace unas semanas cuando la comisión de cultura visitó el museo etnográfico

entendemos que en el punto número cuatro cinco cuando hablamos de reconocer

e instamos al gobierno vasco a que realice una mayor difusión de dicha herramienta

puedan incluir en la misma sus fondos nosotras queremos hacer un apunte y queremos que

y que no solo y que además vele por la dotación suficiente de los recursos para mantener en estado óptimo la difusión y exhibición

y entendemos además que para ello el centro de museos gestiona el registro de museos y colecciones y fomenta sus actividades mediante subvenciones además de coordinar la documentación gestión y difusión de los fondos museísticos sería más conveniente desde nuestro punto de vista

se habla del carácter diverso y de las nuevas gestiones de innovación es evidente que tenemos una oportunidad no solo de mejorar las herramientas que tiene el gobierno vasco sino de actualizar y aplicar la innovación

ya se viene aplicando y hacerlo desde la administración pública así que por ello agradecemos al resto de grupos su disposición para firmar y esperemos que sea una oportunidad para mejorar las políticas que se vienen realizando hasta ahora nosotras nos vamos a mantener

las herramientas de las que el departamento de cultura y política lingüística del gobierno vasco se ha dotado funcionen de una forma activa y constante mila esker

señora presidenta yo creo buenos días a todos y a todas yo creo que ha quedado bastante bien explicitado cuál fue el origen

barrio en cuanto al acuerdo unánime que hoy nos trae

museística en euskadi no voy a reiterar la voluntad y la unanimidad que se ha mostrado y se verá en todos los discursos

por gestionar y optimizar esa red de museos que tenemos en euskadi y en los tres territorios y hacerlo en colaboración con todas las instituciones implicadas para nosotras los museos finalmente son aquellos museos máquinas del tiempo que nos permiten acceder a unos depósitos de imaginación de sabiduría

que primero lo tuvo su creador en primer lugar y luego lo tendremos nosotros y nosotras

de museos locales de una amplia red de museos locales en número

que tienen ya todos una cierta trayectoria y que viven más allá ya de una inicial declaración de intención

de principios y declaraciones en la promoción de los museos y colecciones esconden muchas veces en el inicio aspectos

gestión y mantenimiento pero yo creo que ciertamente y por eso la adopción

interinstitucional la creación de esa red de museos y colecciones y una atención integral y coordinada de los mismos es lo que precisamente permitirá mantener esa oferta cultural porque al hablar de museos locales de colecciones de la pluralidad que existe y que integra la cultura vasca

creemos que dar el apoyo institucional por ejemplo a nuestros museos aquellos sobre todo que recogen e impulsan nuestras tradiciones culturales

es consustancial a la responsabilidad que atiende y debemos de atender las instituciones vascas es posible que así los museos locales atendiendo a una gestión

no terminen siendo menos simulacros que se enseñan a los turistas a los que los nativos no asisten sino que también sean utilizados y gestionados en favor de la cultura y de la formación de la ciudadanía vasca también

nosotros y nosotras por eso defendemos el valor que una red de estos museos y colecciones bien gestionada y ordenada y con un carácter interinstitucional esa coordinación puede hacer en favor no solo de la cultura sino también de la formación de la ciudadanía

de la transacción finalmente llegada a cabo que es el que aportaba el grupo eh

hacer la reflexión de esta red local de museos de todos estos museos que tenemos abiertos y al servicio de la ciudadanía en el territorio de nuestro país en función o con las gafas

nos permitirá cumplir con aquellos retos que finalmente son los que se nos

hay que hacer que esos museos que ya son atractivos porque están relacionados con todo aquello

y demuestran parte de lo que nosotros entendemos como integrante de nuestra cultura y de nuestra forma de ser adquieran dinamismo

y educativo se adopte una actitud crítica

la formación y la información sobre estos foros de cultura de educación

que fuimos de lo que somos y de lo que seremos agradezco a todos y a todas las que han hecho posible la transacción

portavoz de podemos señor martínez podría haberse

el acuerdo permite que se siga trabajando dentro de esos órganos que mantienen de colaboración las distintas instituciones y que es necesario tenerlos en cuenta porque es la mejor manera de organizar un país en el que existen diversas instituciones con competencias distintas sobre la materia creo también que es positiva la nueva dimensión o la nueva perspectiva que en el número cinco se le da al

aportado por el grupo de elkarrekin podemos y entiendo que perfecciona

museística espero que no se quede en una simple proposición no de ley y tengamos la oportunidad de ver los frutos de todas estas iniciativas sobre todo insisto porque los retos que le queda a la

museístico y sobre todo en aquellos museos

en la identidad cultural de los pueblos son muy difíciles de salvaguardar si no tomamos medidas en este momento muchas gracias eskerrik asko

este museo es fruto del trabajo desinteresado y altruista de las personas del municipio de artziniega

principalmente al valle de ayala donde se encuentra ubicado este museo aipatutako museoek

gizarte osoa inplikatuta eta denon ardura izan behar dugula los museos etnográficos son un testimonio vivo de nuestra historia y deben ser una actividad viva trasformadora participativa e interactiva vinculada a la sociedad

de forma que el patrimonio que no se conoce no se llega a valorar de ahí la importancia de las iniciativas locales

surgidas de una iniciativa ciudadana y surgidas en el entorno natural iniciativas ciudadanas y asociativas que mantienen viva

vivo hasta nuestros días arestian aipatu denez

ley de museos de este parlamento vasco del año dos mil seis regula en su articulado las funciones y responsabilidades que corresponden a cada institución en la política museística

responsabilidad compartida entre nuestros tres niveles institucionales gobierno vasco diputaciones forales de los tres territorios y los ayuntamientos esta concurrencia entre diferentes instituciones no debe dar lugar a la existencia de duplicidades

deben ser complementarias y no coincidentes cada institución debe responsabilizarse y asumir las consecuencias de las exigencias que la

al gobierno vasco le toca impulsar programas que permitan a los titulares de museos bien públicos o privados el desarrollo de proyectos dirigidos a reforzar

al fomento de programas educativos o divulgativos con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía en su conocimiento

la ley de museos es muy clara en este sentido cuando recoge en su articulado que la administración colaborará con el resto de instituciones y administraciones

de euskadi y de sus fondos en orden a este artículo se contemplan las convocatorias anuales de ayudas a los museos estableciendo unas acciones muy concretas que debe apoyar económicamente el gobierno vasco

departamento documento de acción de la colección actualización de la exposición permanente exposiciones temporales actividades didácticas y lúdico culturales trabajos de investigación edición y traducción de contenidos científicos mejora de la gestión e impulso de la innovación en definitiva

con el objetivo de dotarse de una regulación global dotando a euskadi de infraestructuras y servicios museísticos modernos coordinados y de plena accesibilidad para el conjunto de la ciudadanía

los recursos y medios que el conjunto de las administraciones públicas destinan a estos museos y para llegar a esta optimización la vía es trabajar de

reforzando la complicidad con diputaciones y ayuntamientos y profundizando la gobernanza compartida y el trabajo en común optimizar los recursos repito y evitar la existencia de duplicidades en la gestión de esa

desarrollando políticas públicas complementarias y no coincidentes ya se ha dicho previamente pero hemos de

solo los museos locales son del orden de más de cuarenta y cinco

mencionados anteriormente también tenemos por sus características singulares excepcionados de este programa ordinario los museos como el guggenheim y el bellas artes de bilbao el artium de vitoria el museo balenciaga de getaria

en los que se interviene de una manera diferente en cada uno de ellos según las necesidades aunque participando en las fundaciones y con una financiación

el grueso restante reciben de diputaciones y ayuntamientos o entidades

no siempre suficientes para gasto corriente y funcionamiento pudiendo a su vez acudir a los programas de ayudas para objetivos concretos establecidos en la ley de museos

su presentación a estas ayudas a variado en el tiempo entiendo que como

se debiera de dar una regularización de las relaciones de esta asociación y la corporación municipal para el aseguramiento de los gastos del funcionamiento

pudiendo implementarse con las ayudas de diputación y presentación

y para finalizar poner en valor el acuerdo alcanzado entre todos los grupos hemos tenido ocasión de hacer una reflexión compartida sobre

y bueno los puntos de la enmienda transaccional ya ha dado el señor barrio cumplida cuenta

y bueno trabajaremos para ir dando

que se han mencionado en relación con lo que es el universo museístico de este país y para finalizar explicar por qué

porque apuntamos que la publicación del catálogo tiene que ser en el dos mil diecinueve porque la última publicación fue en el dos mil dieciséis y la del dos mil diecinueve recogería los datos los datos del

en su conjunto es bianual pero la publicación es en el año posterior eskerrik asko

voy a comenzar por las últimas palabras de la señora betolaza porque sí que es verdad que era una enmienda que habíamos introducido nosotros y me auto enmiendo porque después de realizada la misma y estudiado cual era el proceso

sí que es verdad que es como usted lo ha explicado ahora finalmente por lo tanto por eso ha sido recogido la fecha de dos mil diecinueve

dentro de los museos y colecciones según tipología y territorio histórico

por lo menos los museos etnográficos son los terceros museos más abundantes en dichos territorios en bizkaia la situación es diferente pasan a un quinto puesto pero en ese sentido creo que tienen una importancia pues bueno notoria en los territorios históricos de la comunidad autónoma vasca

recoge que los fondos museísticos estables según la clasificación temática los que tienen que ver con etnografía y antropología están situados

en segunda están situados

en segunda posición detrás solamente de los museos de ciencias naturales por lo tanto también

dichos museos etnográficos pues tienen una importancia como decía

en esta parte de nuestro país pero sin embargo no se recoge y creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo

que va un poco en la línea de las cuestiones que se han recogido en el acuerdo que hoy estamos

tratando como tercer elemento estaría la función social de los museos la tipología de los museos es tan diversa y cumple funciones tan diferenciadas

no son lo mismo aquellos muesos que funcionan como un reclamo turístico de primer orden y tenemos varios en nuestro país o los que cumplen sobre todo una función de custodia y conservación de fondos

por lo tanto suponen una oferta de segundo orden en las localidades donde estas se sitúan estos

deberíamos analizar cuál es la función social que estos museos deben o podrían ocupar gainera ez da nik

jose muñoz sailburuordea dena bertan jasotzen du es necesario pensar en la manera de llegar a un escenario mejor estructurado y más acorde con la filosofía con la que se articuló la ley

para llevar a una nueva reunión del consejo un documento con el que el consejo pueda hacer una reflexión y unas propuestas esa reunión podría hacerse en el mes de septiembre de este año

después pero tampoco se llevó una propuesta en la cual el consejo asesor se había acordado que era necesario trabajar conjuntamente con el resto de instituciones

tampoco se ha llevado dicha propuesta y no hay un documento y por lo tanto y ya pasando al cuarto elemento que quería poner hoy aquí encima del debate

la segunda de las propuestas que recogíamos en nuestra enmienda a la totalidad que es la sexta que ha sido recogida finalmente

la transaccional que hemos firmado de manera unánime y aprovecho también para

tan amplio y consensuado y que hablábamos que teniendo en cuenta el carácter diverso de los museos y colecciones de araba bizkaia y gipuzkoa que se encargue un estudio basado

por lo tanto nos parece que cualitativamente esta aportación a la transaccional que hoy hemos llegado es muy importante porque

dicho informe en base a las nuevas museologías y nuevas formas innovadoras de gestión cultural de dichos museos que atiendan también como decía

a la función social que algunos museos pueden ocupar en aquellas localidades en las que se sitúan porque y para terminar

el informe de museos y colecciones estadísticos que hace el gobierno vasco de manera bianual conjuntamente con el

bai sí gracias presidenta con su permiso desde el escaño solamente para
agradecer al señor estarrona a la señora garcía la señora betolaza y la señora romero la disposición desde luego al acuerdo ha sido

que hemos sido capaces de reflejar en el contenido de la enmienda de transacción aprobada por unanimidad y firmada por todos desde luego que

esperemos que lo sea tractora de actividad de actividad museística pero sobre todo de actividad cultural yo creo que es una buena oportunidad en los seis puntos que hemos aprobado hay muchas cosas que se tienen que hacer y desarrollar

a la actividad seguramente el consejo asesor de museos o del propio observatorio de la cultura pero en ese sentido yo creo que es

que el gobierno se lo tomará no nos cabe duda en serio estaremos pendientes desde luego de cómo se vaya desarrollando pero sí que hay cuestiones

como los informes requeridos y la formación de esa red de museos etnográficos que yo creo que puede ser muy modernizador que puede mejorar desde luego la situación de los mismos y que puede dar medidas desde luego de

dicen que allá por los años sesenta

se formó delante de la embajada británica una de esas manifestaciones espontáneas que el régimen promovía cuando quería tapar algún asunto interno el lema como no podía ser otro era aquel de que nos devuelvan gibraltar y mientras ahí estaban cientos de personas gritando

dice la leyenda política que el ministro del interior de turno

oiga señor embajador quiere que le mande más policía y el embajador con la correspondiente flema británica le respondió no me conformo con que no me mande más manifestantes yo creo que algo parecido deben pensar los comerciantes de este país cuando el gobierno vasco vino a ofrecerles su ayuda es decir bueno la ayuda está bien pero me conformo con que no nos perjudiquéis más

la acción del gobierno vasco o la omisión del gobierno vasco hacia el sector del comercio están generando problemas

el plan territorial sectorial de creación de suelo para equipamientos comerciales un tema que no es nuevo pero que esperemos que hoy tenga un punto de inflexión y el segundo son las órdenes que regulan las ayudas y los programas de promoción

onartuta izan daitekeena eta lehengo planaren helburu berberak bete dezakeena el tribunal supremo reconoce que entre las razones aceptables para establecer restricciones al establecimiento de nuevos grandes centros comerciales están aquellas relativas a las protección del medioambiente y del entorno urbano incluida la planificación y rural no se pueden utilizar otro tipo de criterios que puedan contravenir la directiva europea de servicios la famosa directiva

de servicios en el ámbito de la unión europea y lo que el supremo viene a decirnos es que precisamente los criterios utilizados en el plan territorial sectorial

limitaciones para un reparto territorial entre las diferentes marcas así como para incentivar la implantación de establecimientos comerciales de menor tamaño esto es lo que no se acepta no se consideran razones de interés general y por tanto se anula el plan territorial sectorial añade una nueva cuestión y es que

de equipamientos comerciales deberían motivarse suficientemente en la ley que las establezca y al plan territorial sectorial como no se le corresponde el rango de ley se pone en cuestión

territorial sectorial per se y sin el respaldo de una ley de rango superior pueda establecer estas limitaciones y por tanto el supremo lo que nos dice es

ni las razones esgrimidas son razones aceptables era berean esaten digu hau

aldaketa juridikoak ez egiteko udalerrietan hau posiblea ez egiteko decíamos que las razones que se aceptan en términos jurídicos para establecer limitaciones a la implantación de nuevos grandes centros comerciales

con el medio ambiente los derechos sociales o la ordenación del territorio que no se puede incluir como objetivo expreso de estas regulaciones la promoción de una determinada

pero existiendo razones de peso de orden urbanístico y de ordenación del territorio para establecer estas restricciones a la implantación de nuevos centros comerciales es evidente que además

efecto secundario una mayor protección del sector del pequeño comercio que pensamos que efectivamente requiere de esa protección

económica ordinaria supone un plus un plus para la sociedad un plus para el modelo de ordenación urbana un plus para las relaciones sociales

que debe ser protegido y no atacado por los poderes públicos nos oponemos

para proteger los espacios naturales y luchar por un territorio menos denso desde un punto de vista urbanístico para evitar la construcción de nuevas carreteras

que suponen un gasto económico y también una mayor ocupación del territorio para limitar los desplazamientos en automóvil por evidentes razones medio ambientales

y el comercio local porque no promovemos la desaparición de los grandes establecimientos comerciales

para la cual existe una demanda pero consideramos que esa demanda está actualmente satisfecha con el modelo actual y con el reparto actual y por tanto lo que queremos es que ese equilibrio no se rompa

y también queremos posibilitar la existencia y la pervivencia de un comercio de proximidad que dé servicio a personas que no puedan o no quieran desplazarse en automóvil y que progresiva desaparición del pequeño comercio cada vez tiene más difícil a acceder a compras de productos básicos

no benefician a la economía ni a la sociedad porque con el señuelo de la creación

acaban destruyendo muchos más puestos de trabajo en el sector del pequeño comercio la demanda del comercio no es una demanda

a una multiplicación de la oferta no se va a comprar más mayores centros comerciales ni se va a dinamizar con ello el comercio para que haya mayor consumo para reactivar el sector del comercio lo que hay que hacer es mejorar el poder adquisitivo de los sueldos y de las pensiones y ahí sí que se notará un incremento en todos los sectores

de nuevos centros comerciales que está encima de la mesa tal y como señalaba y mostraba en el gráfico anterior no va a generar una multiplicación equivalente de la y por tanto primero destruirá una buena aparte del pequeño comercio y después además hará que algunos de estos centros comerciales no sean viables porque esa duplicación de la oferta de la que estamos hablando en el área de donostialdea por ejemplo es inviable también desde un punto de vista de sostenibilidad en términos económicos y de beneficios

y mucho más la periferia los barrios y los pueblos y no hay que olvidar además que detrás de estos centros comerciales hay muchas veces operaciones puramente de índole urbanístico

son propiedad de grandes empresas multinacionales extranjeras que tributan fuera de este país y que afrontan el negocio no como una forma de aportar al sector del comercio sino simplemente como puras operaciones especulativas de índole inmobiliario defendatu behar dugu

en la segunda intervención es la cuestión de las órdenes que regulan los programas de apoyo al comercio unas órdenes cuyo late motiv expreso en esta convocatoria la convocatoria de este año

que representan a los comerciantes en particular al pequeño comercio puede ser necesaria una reflexión sobre el modelo asociativo desde luego que es una reflexión necesaria sobre cómo el comercio debe hacer

nuevos hábitos de consumo y nuevas tecnologías pero esa reflexión ese trabajo hay que hacerlo no al asociacionismo existente sino conjuntamente con ese asociacionismo es probable como decía es urgente que se dé esa reflexión pero esa reflexión debe ser una reflexión

de este año se eliminen aquellos aspectos que favorecían el asociacionismo y que hacían que esas asociaciones y esos grupos que están luchando de forma denodada y muy meritoria por la pervivencia del pequeño comercio pudieran tener una serie de disposiciones

que les ayudarán a mejorar su trabajo no se va en la buena dirección en la actitud de este gobierno no es la primera vez

con la liquidación vía decretazo de ikusmer y esperemos que esta proposición que hoy

para que evidentemente el gobierno se ponga las pilas en estos dos ámbitos necesitamos un nuevo plan territorial sectorial un plan que restrinja la implantación de nuevas superficies que se nos presente con un calendario definido para su culminación

superficies comerciales hasta que este plan entre en vigor necesitamos cambiar la ley de actividad comercial para reforzar el alcance

a los requisitos de la legislación europea y a las condiciones expuestas por el propio tribunal supremo y necesitamos también un gobierno más cercano a las asociaciones

el asociacionismo y no tenga como objetivo restringir o limitar

se sostiene a un sector vital como es el del pequeño comercio eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna

eh bilduk aurkeztutako legez besteko proposamena eztabaidatzen dugu quisiera comenzar mi intervención recordando que ya han pasado más de dos años desde que en marzo de dos mil dieciséis el consejo de gobierno

la tramitación de la revisión del plan territorial sectorial de actividades económicas

en cumplimiento de la sentencia del tribunal supremo de tres de septiembre de dos mil quince fallo que declaraba nulas de pleno derecho las determinaciones

a la superficie máxima para equipamientos comerciales epaia betetzeko eusko jaurlaritzak baliorik gabe utzi zuen jarritako

se dice reconocer y valorar el pequeño comercio pero la pasividad la lentitud en legislar y por otra parte la supuesta prisa en las recalificaciones contrasta con estas declaraciones de los partidos que sustentan el gobierno insisto llevamos más de dos años sin ningún límite legal

establecimientos comerciales con lo que ello supone de inseguridad jurídica como por desgracia suele ser habitual

plazo alguno pero lo que es más preocupante es un mero calco al acuerdo adoptado por el gobierno vasco en marzo de dos mil dieciséis hace ya más de dos años

un consenso más pronto que tarde sobre la necesidad de regular y establecer limitaciones a las grandes superficies comerciales pero estamos de acuerdo al cien por ciento

con las asociaciones de comerciantes en que el camino más recto y el que otorgará verdadera seguridad jurídica es el modificar el artículo trece de la ley vasca de actividad comercial y así lo entiende también el tribunal supremo

y leo textualmente que la ley diecisiete barra dos mil nueve exige además que las restricciones a la implantación de equipamientos comerciales deben motivarse suficientemente en la ley que las establezca obligaciones o requisitos ambos que no se cumplen en el plan territorial sectorial ya que ni tiene rango de ley ni justifica suficientemente el cumplimiento de las condiciones

se desprende que la nulidad de pleno derecho se debe más a un defecto de forma que de fondo es decir no se puede limitar la apertura

razones económicas pero en el fondo sí se pueden limitar por razones ecológicas

o de ordenación del territorio y lo que es mejor

el camino a seguir extrayendo dos conclusiones la primera que los motivos se deben de establecer en un texto normativo con rango de ley

no es el instrumento legal adecuado para establecer

por lo tanto hay una cosa clara si no se modifica el artículo trece de la ley de actividad comercial esto queda como una mera declaración de intenciones de palabras más o menos bonitas pero vacías de contenido y es lo que pedimos hoy al gobierno pero dadas las circunstancias

elementos para confiar en el ejecutivo gauzak horrela aipatutako artikulua egokitzeko euskaldendak elkarteak pasa den astean

lasai egon daitezke dendari txikiek y como decía tengo que agradecer a los grupos que hemos consensuado

enmienda de transacción al partido popular y a eh bildu con el señor casanova y con la señora lópez de ocariz porque nos hemos reunido en varias ocasiones con las asociaciones de comerciantes y ellos

y les hacemos llegar esa preocupación esa preocupación por defender su puesto de trabajo sabemos que el pequeño comercio genera vida genera vida

construir muchos más centros comerciales y por supuesto que necesitamos seguridad jurídica y la seguridad jurídica la necesitamos a través de la ley de esa modificación del artículo trece de la ley de actividades comerciales y son ellos realmente nos han facilitado mucha de la documentación y son ellos mismos los que nos han propuesto realizar una modificación de la ley de actividades económicas y comerciales

próximamente registraremos una modificación de la ley porque pensamos que están en su perfecto derecho están defendiendo su puesto de trabajo y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar solucionar un problema que parece que está enquistado o atascado no sé cuáles son los canales de comunicación

es que no hay aparentemente intención de llegar a una solución viable entre ambas partes por tanto les trasladamos que desde la oposición hemos llegado a un acuerdo con esta enmienda de transacción y vuelvo a repetir

buenos días gracias señora presidenta señores consejeros señorías ya lo hemos dicho

sea necesario la actividad comercial es un factor determinante en el nacimiento y el desarrollo de las ciudades y los cascos urbanos

básico de nuestro modelo de vida social es un animador de las ciudades insustituible

favorece las relaciones sociales y potencia la vida ciudadana el sector del comercio representa un sector estratégico en euskadi aportando el trece coma sesenta y ocho por ciento

los comerciantes trabajan con ahínco para atraer y retener

maduro e informado actividad privada que levanta todos los días la persiana de su negocio para realizar su actividad

la razón de proximidad que durante tantos años marcaba la elección de un lugar

únicamente una proximidad física es una proximidad de oportunidad porque hoy podemos comprar cualquier cosa en cualquier momento y esto es un cambio

físicos seguirán jugando un papel principal pero para competir

nuevas fórmulas para hacer más fácil y cómoda la vida de los clientes ofrecer nuevos elementos de valor añadido y complementar el establecimiento tradicional por ejemplo con aplicaciones digitales

a la más grande empresa afrontan el reto de innovar para avanzar innovar significa ser muy conscientes de al menos tres cuestiones primero que hay que adaptar continuamente la oferta a una demanda cada día más

el objetivo y tercero que hay que aprovechar al máximo las nuevas tecnologías las nuevas plataformas

marca una ventaja competitiva indudable y en esta tarea todos

jugamos un papel fundamental debemos ser capaces de promover estrategias innovadoras mejorar la logística de nuestro sector comercial y acoger a tiempo la revolución digital en los últimos dos siglos

la máquina de vapor hace doscientos años y la de la electricidad cien años y estamos ante la revolución que nos ofrece nuevas oportunidades y a la que nos debemos de subir y especialmente el comercio por otro lado nos encontramos ante una tendencia de vuelta de la

se plantean actuaciones de dinamización comercial de proximidad especialmente en las zonas urbanas con una baja densidad comercial buscando la garantía

en nuestros pueblos y ciudades actuaciones en las que los colectivos asociativos son los que están próximos al empresariado comercial siendo los mejores canales con los que se puede contar para capitalizar las diferentes políticas

comercial desde el grupo popular siempre hemos plasmado nuestro interés en fortalecer el sector comercial minorista unos ejercicios hemos tenido

y ante la ley de presupuestos hemos presentado enmiendas aumentando

un dieciséis coma cinco por ciento el presupuesto de la dirección de comercio

de las partidas de hirigune para que y como medida de choque las asociaciones de comerciantes pudieran contar con más fondos para activar el tejido comercial

especialmente en los barrios y siempre bajo el prisma de colaboración público privada

y para que se pudieran subvencionar los costes de gestión de las asociaciones con oficinas dado que tienen que atender a todo el comercio de su área de acción

sin embargo y obviando el respeto debido a este parlamento el gobierno vasco ha divulgado unas órdenes de ayudas en materia de comercio en las que se cambia

con el claro y único objetivo de perjudicar a las asociaciones de comerciantes

y con el apoyo de la inmensa mayoría de las asociaciones de euskadi se alteren de tal forma que se vuelvan contra el asociacionismo así

contempló y se aprobó en los presupuestos que todas las entidades beneficiarias del programa perciban la misma subvención del cien por ciento de la base imponible el borrador propone la financiación del ochenta por ciento y se cambia la redacción de la orden preexistente

que existía para la adjudicación de los fondos sobrantes hacer imposible lo que el parlamento aprobado ese es el objetivo de las modificaciones

el borrador contiene dos modificaciones sustanciales la dotación aprobada para este año permitía mantener cuarenta y dos oficinas subvencionadas al cien por ciento

treinta y nueve oficinas subvencionadas al ochenta y cinco por ciento se permite que nuevas entidades que hasta ahora no han sido beneficiarias puedan acoger dichas oficinas como son las cámaras de comercio los ayuntamientos y las agencias de desarrollo

asociativas que vertebran el sector en favor de entidades públicas cuya relación con el sector

institucional y distante y no sectorial señorías oficinas

han tenido un contacto de actuación y de ejecución de proyectos en torno al sector comercial minorista urbano respecto al programa modernización y estructuras la orden se modifica reduciendo un ochenta por ciento de cinco a uno la valoración del asociacionismo estar asociado aquí

el asociacionismo y se debilita el tejido asociativo en cuanto a la formación

y es complicado mantener el grado de adaptación necesario para ser competitivos y es por esto que es imprescindible estar formados en las diferentes disciplinas

por eso no se entiende que desde el gobierno se eliminen los recursos para mejorar la capacitación de este sector empresarial el sector del comercio se pueden readaptar los programas divulgativos pero nunca en su lugar qué se propone pues se propone un nuevo programa sobre emprendedores en planes pilotos con ayuntamientos

para esto que no se sabe qué es y para empresas

que serán seleccionadas por el departamento no se esconden lo dicen claramente nosotros elegimos con quién y para qué

luego no hay nada lo que sí hacen es quitárselo a las partidas que van directamente al sector comercial programa desconocido por los ayuntamientos

desde luego el comercio no está aquí por lo menos no se ve

todas estas modificaciones suponen que los fondos del comercio vayan a puestos de los ayuntamientos a agencias y cámaras de comercio así como a empresas que el gobierno

y que pretenden controlar el sector arrinconando el

hacer política con los recursos que la ley de presupuestos destina al sector del comercio minorista a su formación y a su adaptación a la revolución

señorías esto es lo que tenemos sobre la mesa y la ejecución o lo que propone el gobierno para el sector del comercio reducir lo que se aprobó en esta cámara en la ley de presupuestos eso es lo que se recoge

y de acuerdo con la enmienda que hemos aprobado los tres grupos eh bildu y podemos pedimos porque lo creemos y porque es obligado cumplir la sentencia que hay que modificar la ley tal y como dice la sentencia para hacer un plan territorial sectorial que sea legal y además pedimos que se establezca una vía de comunicación y transparencia y trabajo con los representantes del sector del comercio del país vasco para avanzar en la modificación del pts de equipamientos comerciales

y esta planificación hay que hacerla con el sector no en contra del sector y porque en este departamento especialmente

en contra del sector comercial no sé qué les ha hecho a ustedes el sector comercial pero francamente lamentable la actuación que se está teniendo no hay una relación fluida y las que hay son de humillación y lo digo así y creo que no me equivoco nada y ahí están los representantes del sector

y son humillados también otros agentes que se relacionan con este departamento amaitzen joan

egun on bienvenidos a los visitantes que están hoy con nosotros del sector del comercio vamos a ver

por empezar con lo que nos traía aquí el proponente dela iniciativa el señor casanova decía que hoy

y no señor casanova el punto de inflexión se empezó a dar el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis cuando usted perdió la iniciativa que planteaba aquí respecto

todas y cada una de las propuestas que usted hacia el diecisiete de marzo del dos mil dieciséis

supuso la respuesta que le dio el consejero de medio ambiente planificación territorial y vivienda a la pregunta que usted le hacía en febrero de dos mil diecisiete eso sí empezaba el punto de inflexión y en esa respuesta le decía cómo estaba el departamento trabajando el asunto de la revisión del pts cómo estaba el documento de avance de revisión

y cuáles iban a ser las pautas y los tiempos que tenía ese avance y cómo se iba a dar la información y exposición al público y cuándo finalizarían esa información al público y cuándo se pretenderían tener las conclusiones ese era un punto de inflexión no lo que usted está diciendo y haciendo hoy aquí señor

comenta de una moratoria jurídica y una moratoria política yo estoy un poquito en fin saturada de empezar a oír adjetivar los sustantivos lo digo porque como también he empezado oír hablar del tema del concierto político en lugar de económico

me chirria dice usted que es para evitar que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi sigan dando pasos para posibilitar los equipamientos comerciales

consejos vendo pero para mí no tengo y le hablo del tema de oiartzun de usurbil de la legislatura del señor izagirre en el ayuntamiento de san sebastián con los centros de rekalde

en fin para aburrir tenemos también ejemplos

no me lo podrá negar hemos pretendido hacer una posible transacción con ustedes y yo se lo hice por correo como proponente que tenía de la iniciativa sobre el plan territorial sectorial de manera que entendíamos que era necesario que el parlamento manifestase como imprescindible la regulación de la distribución de la oferta comercial para conseguir una ordenación del territorio adecuada

proteger el medio ambiente organizar bien los espacios de las actividades económicas garantizar la accesibilidad de toda la población a los establecimientos comerciales y revitalizar

señor casanova instar al gobierno a que termine lo antes posible

y la ordenación de grandes establecimientos comerciales resolviendo

resolviendo el encaje de la regulación de los equipamientos comerciales con el derecho de la unión europea con la directiva

impide y la que ha hecho anularse los criterios económicos y mercantiles que hasta ahora imperaban en ese

del año dos mil cuatro pretendíamos señor casanova ayer ofreciéndole una transacción que desde el parlamento vasco se instase al gobierno a que la revisión del plan territorial sectorial de creación de suelo para actividades económicas y de equipamientos comerciales

legal y dando seguridad jurídica al consenso conseguido en el año dos mil cuatro sobre la necesidad de regular y establecer limitaciones a las grandes superficies comerciales queríamos señor casanova en la

al pequeño comercio por su aportación en términos económicos y de empleo así como por su contribución como elemento de dinamización y de cohesión social en nuestros pueblos y ciudades porque no solamente lo creemos no solamente hemos puesto

en el programa de gobierno en el programa presupuestario sino que lo practicamos y lo hacemos con el diálogo día a día

de turismo comercio y consumo en el diálogo desde su dirección de comercio

de todo el sector comercial de todo

que no solamente una parte importante es el asociacionismo pero el sector comercial conlleva muchos más agentes que las asociaciones que están ahora mismo regulando o al menos interviniendo en lo que es el comercio minorista

instase al gobierno a que desde el departamento de ordenación del territorio y también desde el departamento de turismo comercio y consumo se mantuviese una vía de comunicación transparente y de trabajo con los representantes institucionales y del sector del comercio del país vasco respecto a esa evolución de los trabajos de revisión

porque no partimos de un kilómetro cero no partimos de que se nos ha caído una sentencia encima y resulta que tenemos que empezar ahora a revisar el plan el plan se lleva revisando ya un tiempo y el plan tiene también su tramitación en marcha por lo tanto creíamos que era necesario poner eso de manifiesto

no ha atendido a nuestros requerimientos de negociación

también que la revisión del plan territorial sectorial en lo relativo a los grandes centros comerciales

primero la existencia de un consenso que se alcanzó en el año dos mil cuatro sobre la necesidad de regular e imponer limitaciones a los grandes superficies comerciales que vigente con los objetivos de desarrollo sostenibles que existen hoy en día

han decaído o se han declarado nulos por el tema de la aplicación de la directiva bolkestein pero no obstante esos trabajos de revisión del plan territorial sectorial con esa premisa de la existencia

otra de las premisas es la exigencia legal y jurisprudencial de orientar la planificación territorial sectorial a ese objetivo de atender exclusivamente a razones medioambientales y de ordenación del territorio por criterios sostenibles

aquí su importancia van en consonancia con esa revisión del plan territorial sectorial respecto a la modificación del artículo trece de la ley de actividad comercial que ustedes plantean en esa transacción que hoy nos han traído aquí

se justifican y la justifican ustedes en un refuerzo de la seguridad jurídico del pts a nosotros no nos parece que esa sea la formulación más adecuada porque la seguridad del pts viene expresada de manera clara y expresa

con la regulación contenida en ese propio plan territorial sectorial

para mayor seguridad jurídica que este es un instrumento el pts de ordenación territorial definidor

en el ámbito de la comunidad autónoma y la ley de actividad comercial contempla y plantea criterios de proporcionalidad y de adecuación a la implantación

de la movilidad de la incidencia sobre la ordenación urbana y de respeto medioambiental del ámbito territorial en el que se pretende su implantación

resultan ajustados por el momento para asegurar la actividad comercial en sí misma y también para lograr la sostenibilidad de esa actividad comercial y también para asegurar el necesario equilibrio entre el comercio de proximidad

ha comentado antes señor casanova mire dicen quienes

esta propuesta supone la superación del marco regulatorio que dispone actualmente

porque se estima insuficiente para la correcta ordenación urbanística y territorial de la actividad minorista y yo digo

al regular los grandes centros comerciales se basaba en dos objetivos

eran consustanciales y sustanciales y además ambos eran de interés público un objetivo es el de precisar el equilibrio entre el gran mediano y pequeño comercio es el motivo básico contemplado en la parte expositiva de ese plan por lo tanto en la ordenación urbanística que corresponde al pts está planteada la seguridad jurídica del equilibrio entre los modelos comerciales

la superación de esa regulación a través de la modificación de la ley de actividad comercial

como pueden hacerlo otros igual digo yo

no vaya a conllevar en un futuro una modificación de la ley de actividad comercial y quizás ni en todo el artículo trece o igual en todo el artículo trece y en algún artículo más de la ley de actividad comercial o incluso pudiera conllevar alguna modificación

por lo tanto hay muchas incógnitas todavía hasta que se vayan dando pasos y resolviendo como digo yo este tema en base al encaje legal y como no me queda prácticamente nada de tiempo luego lo comentaré en el segundo turno respecto a las asociaciones de comercio

sí me gustaría decir que tanto el gobierno vasco como los socialistas vascos llevamos mucho tiempo

lo pueden demostrar nosotros el contacto es continuo con las entidades y con las asociaciones el hecho de que haya algunas discrepancias

aires de radicalidad para decir que el gobierno está

qué consideran ustedes que hacemos aquí que nos dedicamos a tirar no sé por el suelo las actividades del asociacionismo luego se lo explico en el segundo turno porque tengo para cada uno de los puntitos que han

tengo la explicación y además no es demagógica ni populista se trata de decir la verdad de lo que hay y de cuál es el futuro pero eso sí les aviso esto temas no se los han sacado de la manga amaitzen joan sí

este tema de las órdenes de ayudas no se las ha sacado de la manga consejero de turismo comercio y consumo están explicadas en las líneas estratégicas cuando tuvo la comparecencia en este parlamento de su departamento están explicadas

presupuestarias y verá ahí por dónde y porqué esas órdenes y esas ayudas

y los socialistas también lo sustentamos como partidos al gobierno y ahí están explicadas el porqué del apoyo al sector comercial y también a las entidades y asociaciones nada más y muchas gracias

la regulación de la distribución territorial de la oferta comercial para entre otras cosas conseguir una adecuada ordenación del territorio realizar una planificación correcta del transporte y las infraestructuras proteger el medioambiente equilibradamente los espacios para las actividades económicas garantizando la accesibilidad de toda la población a los establecimientos comerciales y revitalizar

ya los ha señalado y los ha puesto de manifiesto la señora corcuera pero evidentemente en relación al pts pedimos

rápida para que se termine lo antes posible para resolver como efectivamente la señora corcuera decía el nudo gordiano de toda esta cuestión

de los equipamientos comerciales en el derecho de la unión europea dar un encaje legal y jurídico que es algo muy importante al consenso conseguido en el año dos mil cuatro sobre la necesidad de regular y establecer límites regular y establecer límites esa es la idea

en aras a conseguir lo que comentaba antes de ese equilibrio necesario e imprescindible entre los grandes centros comerciales y el comercio

por tanto nosotros en relación a ese primer punto no tenemos ningún problema tampoco en el segundo establecer un cronograma dentro de tres meses pues tampoco nos parece que sea una cosa complicada en la medida en que nosotros también sí que propugnamos y el propio gobierno es la voluntad

de ir lo más aceleradamente posible pero también sobre bases legales y jurídicas estables y sólidas y seguras en la aprobación

y en ese sentido pues la verdad es que tampoco tenemos decía el encaje de los preceptos de la unión europea y más concretamente de la directiva de servicios del año dos mil seis

yo creo que es un poco lo que la segunda parte del punto dos de la transacción del partido popular

viene a señalar alude al tribunal supremo y a su sentencia del tres de septiembre del quince y luego alude al tribunal de justicia de la unión europea que no sé si igual habría que eludir mejor

que habla efectivamente de razones imperiosas de interés general la ordenación del territorio la protección del medioambiente la protección de los consumidores la protección del patrimonio artístico y cultural que eso es posible hacerlo

en general siempre que no supongan o no encubran una planificación económica en relación al punto tres yo creo que la señora corcuera lo ha explicado bien nosotros evidentemente reiteramos una vez más

lo que tenemos son muchas dudas jurídicas en relación

es decir nosotros pensamos que en un principio

para luego a continuación modificar la ley de actividad comercial tenemos dudas jurídicas sobre lo que se nos plantea

nuestras serias reservas en cuanto al punto cuatro

establecer una moratoria yo creo que desde el punto de vista jurídico es extraordinariamente complicado e incluso también desde el punto de vista político hay que tener en cuenta que

a la hora de emitir su informe que es preceptivo que no es vinculante pero sí es preceptivo a la hora de otorgar unas licencias para el establecimiento de nuevos centros comerciales

el gobierno no podría de una manera deliberada y consciente

la emisión de sus informes so pena de verse denunciado ante los tribunales por lo tanto tenemos nuestras serias dudas de que un precepto o una idea como esta sea viable otra cosa es

a todas las instituciones involucradas para que tengan en cuenta las razones de interés general a las que eludía anteriormente a la hora de proceder

que es a lo que nos llevará creo yo en definitiva la modificación

de la ley de actividad comercial bueno se hablaba del consenso nosotros estamos en el consenso señora zabala estamos en el consenso

se nos tiene que llamar y no se nos ha llamado hemos sido nosotros los que una vez más hemos tenido que tomar la iniciativa y no sé actitudes evidentemente respetables legítimas son posicionamientos políticos que me da la impresión que se traducen en aquello de una vez que sé que el gobierno va a perder yo no me molesto en hablar con el gobierno no es nuestra actitud

creo que no ha sido nunca y bueno nosotros también nos hemos reunido con el sector pero no nos hemos reunido con ustedes y no hemos hablado con ustedes y claro dar ya por sentado que bueno no hay ningún tipo de posibilidad de acuerdo pues hombre

cerrarse a abrir una ventana de oportunidad para intentar llegar a un acuerdo y mantener prejuicios sin consultar sin hablar

creo que es una actitud bastante conservadora e inmovilista eskerrik asko eskerrik asko

en esta moción o esta proposición no de ley al texto original se ha incorporado una serie de apartados referentes órdenes y a los decretos reguladores de esas órdenes que suponían de alguna manera una enmienda a la totalidad a la actuación del gobierno y que entendíamos que en ningún caso iban a ser respaldadas por los partidos que sustentan al gobierno porque suponía efectivamente enmendarle la plana al propio gobierno esa es la razón por la que ni siquiera les hemos ofrecido firmarlo porque entendíamos que era absolutamente imposible que los partidos que están sustentando a este gobierno

a una actuación de dicho gobierno pero evidentemente

aspectos relacionados con la reacción de la misma se la hicimos saber y con carácter previo también les advertimos de que se iban a introducir nuevos contenidos para que ustedes el debate de hoy estuvieran en igualdad de condiciones y supieran cuáles eran esos nuevos contenidos que se sumaban a la pnl original decía usted señora corcuera que

he enseñado antes un mapa de todos y cada uno de los proyectos que están en marcha ahora en gipuzkoa yo le acepto el desafío de ir uno por uno mirando la actitud de eh bildu y la actitud del partido socialista en los mismos le voy a poner solo un ejemplo en ursubil

niega la licencia para esa ampliación todas las licencias en donostia no solo se están otorgando sino que se están cambiando específicamente y se están cambiando la normativa para posibilitar que se hagan estos desarrollos comerciales el caso de garbera es paradigmático y en referencia al pnv podríamos hablar por ejemplo

cambio del plan general es decir si ustedes realmente están a favor del mantenimiento del consenso del año dos mil cuatro y de que no se creen más centros comerciales aparte de decirlo aquí aplíquelo allí donde tienen capacidad de aplicarlo

no sé si le molesta lo del concierto político o no a mí no particularmente a usted igual sí pero no vamos ahora a abrir una cruzada contra los adjetivos

porque la moratoria es imprescindible la moratoria se puede hacer desde un punto de vista jurídico y legal asociada a la tramitación y existe respaldo para ello eso es precisamente lo que ha pasado en mallorca y acaba además este mismo mes

superior de justicia de mallorca que ha decidido que es legal mientras se establece

decretar una moratoria pero yo le decía que podíamos ir más allá incluso si hay dudas legales sobre ello y sobre los tiempos decidamos políticamente que no queremos más grandes centros comerciales y deneguemos las licencias con la ley en la mano

a cambiar la normativa urbanística porque se puede hacer allí donde tengamos capacidad para ello

del partido socialista por qué nadie en este país salvo ustedes está tan convencido por eso hemos venido hoy yo decía sí efectivamente un punto de inflexión porque marcamos un tiempo que el gobierno nos presente unos plazos para que este pts esté concluido y unos compromisos

no es concluyente pone encima de la mesa diferentes ofertas y lo que nosotros queremos aquí es una declaración política del parlamento

los tengo en cuenta y yo no los descalifico en absoluto

algo que va todavía más allá de lo que ustedes planteaban es decir calendario contenidos y claridad y eso a la sociedad y al sector del comercio le va a dejar más tranquilo sobre todo si efectivamente el gobierno asume el compromiso

es muy fácil que el gobierno se posicione que diga que recepciona el mandato de esta cámara y que lo asume como propio porque sabe usted que la pnl no tiene carácter vinculante desde el punto de vista legal si ustedes están de acuerdo efectivamente

cumpla el mandato que se hace en esta pnl sobre el cambio de la ley

es que lo dice el tribunal supremo que tiene que estar anclado en una ley de hecho el problema que tenemos se basa en parte en que el consejo de gobierno el año dos mil nueve se negó a adaptar la ley de actividad comercial y luego eso fue lo que les han tumbado entonces no es que lo diga yo mire yo no tengo ni ninguna simpatía

ni mucho menos tampoco por la directiva bolkestein y su contenido pero efectivamente lo que nosotros estamos planteando es algo dentro de la legalidad bien estudiado porque llevamos tiempo con este asunto y nos ha obligado efectivamente a estudiar la jurisprudencia a estudiar lo que dice la unión europea y lo que dice el tribunal supremo y aquí hay una hoja de ruta bien trabajada

que dé seguridad y que mientras tanto no se dé carta blanca a la proliferación indiscriminada de establecimientos comerciales si estamos todos de acuerdo hoy lo dejamos escrito que el gobierno se compromete a respetarlo y efectivamente toda esta gente se irá a casa bastante más tranquila y yo también

lo de la desaparición del pequeño comercio es como el cambio climático está pasando no es algo que puede pasar es algo que está pasando está pasando a un ritmo relativamente lento y por eso casi

el propio plan estratégico al que usted hacía mención recoge la desaparición

hace falta un esfuerzo colectivo muy importante para que el sector del pequeño comercio pueda hacer frente a los retos a los nuevos desafíos nuevas realidades tecnológicas y nuevas realidades en el sector

el gobierno tiene que tener un papel de liderazgo de dinamización junto con las asociaciones del sector lo que no puede venir es a declarar la guerra a las asociaciones a declarar unas órdenes que han puesto patas arriba todo el sector y que no solo la asociación que ha promovido quizás o que esté hoy aquí presente haya promovido las protestas más activas sino también otras quizás en un plano más discreto pues les ha sentado realmente fatal

articular ese diálogo articular grandes consensos y hacer frente

y como decía la señora corcuera no es necesario modificar el artículo trece de la lee que el pts ya proporciona suficiente seguridad

es que lo dice el tribunal supremo y el tribunal supremo nos dice así y leo textualmente

de equipamientos comerciales deben motivarse suficientemente en la ley que las establezca

ambos que no se cumplen en el plan territorial sectorial ya que ni tiene rango de ley ni justifica suficientemente el cumplimiento de las condiciones de no discriminación necesidad y proporcionalidad por tanto yo creo que no somos nosotros es el tribunal supremo

yo creo que es necesario por supuesto en esa orden de prioridad presentar el plan territorial sectorial nuevo lo observaremos y lo estudiaremos habrá que hacer una adecuación de la ley de actividades comerciales modificando ese artículo número trece que es lo que nos están pidiendo los comerciantes y el pequeño comercio

un equilibrio porque tenemos nuevas formas de consumo la sociedad está evolucionando a pasos agigantados y como comentaban tenemos una forma de compra por internet trescientos sesenta y cinco días al año veinticuatro horas al día es verdad ellos no pueden competir pero habrá que gestionar de otra manera para conseguir que ese equilibrio se dé de forma que los pueblos no se queden vacíos

tengan su futuro por lo menos asegurado y que no tengan esas inseguridades que les genera el hecho de que el gobierno está haciendo cosas porque yo sé que ustedes están haciendo cosas pero no saben el qué por tanto yo creo que es necesario abrir esos cauces esas vías de comunicación que

y por supuesto intentar llegar al mejor acuerdo posible que seguro que es en beneficio para todos y todas eskerrik asko eskerrik asko

se dice que se modifica el concepto de beneficiario al permitir a las cámaras competir en el ámbito territorial y a los ayuntamientos y entidades de desarrollo

y además derivado de estos cambios se neutraliza la valoración de aquellos aspectos en los que el baremo de puntuación trata de forma diferente

qué me quiere decir que tienen igual naturaleza jurídica las asociaciones que las cámaras de comercio y que los ayuntamientos que tienen el mismo trato y la misma relación con el sector del comercio urbano las cámaras de comercio que las

esto en qué página del presupuesto aparece en ninguna no se esconde esto lo escribe el departamento y lo que viene es

no se esconde en qué página del presupuesto se dice eso pero es que mire cuando van a los cambios en las ayudas

certificación de excelencia se baja de tres puntos a dos no ustedes desincentivan

a ser excelente porque ya lo quitan de las ayudas perteneciente a una asociación de cinco puntos a uno si tiene software de gestión de cinco puntos

pero esto es incentivar a la modernización del comercio o desincentivar

titulación superior en la plantilla de cinco puntos a dos pero aparte de que eliminan la formación desincentivan a que gente con titulación esté en un comercio

tremendo reconocimiento como entidad colaboradora en igualdad comercio minorista urbano pasa de dos puntos a tres me dice usted cuál es el porcentaje unidad familiar de los comercios minoristas y van a hacer un plan de igualdad entre los miembros de la unidad familiar ya le digo yo cuál es el plan de igualdad que tienen que hacer los miembros de la unidad familiar para atender su comercio ya le digo yo cuál es señoría esto es

a que el comercio se modernice es al revés desincentivar y qué hacemos efectivamente si yo tengo una titulación no puede obtener ayuda me baja la puntuación

que haya un menor gasto de esa partida para luego el sobrante destinarlo a lo que yo quiera además de las partidas que ya se han inventado

a los ayuntamientos a las empresas señorías yo me voy al decreto

y lo que dice dirección de comercio cuáles son las competencias y qué debe hacer la dirección de comercio ordenar la actividad comercial

ordenar no propiciar que haya núcleos desproporcionados ordenar la ciudad comercial segundo

y procesos de distribución comercial tercero fomentar la implantación de procesos de calidad y de innovación en el comercio fomentar no ejercerlas yo no porque esto no es un servicio público

sí sí sí el que levanta las persianas todos los días es un particular que ha decidido ser autónomo

no es un servicio público donde ustedes equiparan a esa actividad con el ayuntamiento o con la cámara de comercio pero cómo se puede equiparar eso neutralizar utilizan neutralizar a las asociaciones

tremendo menos mal que lo escriben porque uno lo cuenta y no se lo cree nadie

tienen el arrojo de escribirlo dice asistencia técnica a las empresas

a través de las redes de oficinas de asistencia técnica del comercio

los ayuntamientos las cámaras de comercio las agencias de desarrollo dónde está esto vale o no vale me dice que tiene firmado usted un papel donde se recoge esto no sé dónde está yo me va a permitir que crea

o no le tenemos que creer entonces si aquí solo figura las asociaciones

para en la red de oficinas de asistencia técnica del comercio

la cámara de comercio los ayuntamientos y las agencias de desarrollo señorías se hacen trampas a sí mismos se les ve el plumero ya lo siento seguramente que hay mucha gente del partido socialista que no está de acuerdo con esto

esto lo tienen que enmendar porque estamos destruyendo el tejido asociativo del comercio que es un elemento prioritario

fuerte claro que sí lo necesitamos pero estas órdenes no fortalecen el tejido asociativo lo destruye eskerrik asko

bueno minutos de gloria y pocas realidades prácticas y lo lamento

de corazón porque me conocen desde hace ya muchos años en la ayuda a las asociaciones y a los comerciantes del sector del comercio en este parlamento

señora lópez de ocariz no hay ni una sola frase de la enmienda que usted planteó ante la iniciativa de bildu que se haya recogido en esa transacción

que tienen ustedes firmada ahora mismo entre bildu podemos y el partido popular nada nada cero pelotero del pts qué lecciones me va a dar usted a mí de ordenación territorial cuáles

no lo digo porque claro es que cuando a uno les da por escenificar y por irse a la radicalidad resulta que otros nos tenemos que quedar aquí comedidos pues va a ser que no vale

directiva bolkestein aquí estamos vendiendo señora lópez de ocariz que vamos a poner límites a la liberalización de los servicios cuando ustedes en madrid deben de estar haciendo algo totalmente distinto algo tendrá euskadi cuando cambian

y lo digo porque igual ante sus compañeros tendrían que hacer también esa reflexión que nos pedían a nosotros bildu defendiendo la gestión de los presupuestos a los que votó en contra enmienda de totalidad

así que votaron en contra de todas las de todas y cada una de las ayudas a todo el comercio

a todo o no señor casanova las órdenes

que usted sabe que esas órdenes no se aprueban en los presupuestos pero léase las memorias de la dirección de comercio interior en cuatro ejes todas y cada una de las líneas estratégicas que tenemos de ayuda al sector comercial y el por qué y la explicación está en el programa de gobierno que hemos asumido también los socialistas que sustentamos al gobierno

porque el sector comercial tiene su importancia en la actividad económica de este país y por lo tanto

que junto con otros factores impulsan y promueven el comercio y por lo tanto impulsan y desarrollarán la actividad económica de euskadi en general cómo vamos a ir contra algunos

del desarrollo comercial de euskadi cómo señora lópez de ocariz cómo y desde cuándo pues nunca pues nunca le voy a decir más en la comparecencia del consejero para explicar los presupuestos del año dos mil dieciocho se venían a dar las claves de cuál era

mire el acta ya lo verá y verá la explicación también del consejero respecto al programa de innovación y como les decía antes respecto a las oficinas

de técnicas de comercio saben las asociaciones y las entidades

introdujo en los presupuestos para estas oficinas resulta que se olvidaron

al año siguiente qué ha conllevado eso un problema presupuestario técnico pero un problema que paralizaba y por lo tanto las ayudas tan solo podían

no para las cuarenta y dos y las acciones del departamento de turismo comercio y consumo

han promovido que al final hacienda y presupuestos del gobierno vasco tenga y permita con una transferencia de crédito la solución para que le veinticinco por ciento del dos mil diecinueve conste en los presupuestos del año dos mil diecinueve desde ahora

por lo tanto corregida esa cuestión pero que ustedes metieron en su enmienda el problema porque no especificaron

a la hora de hacer unas enmiendas respeto

es verdad que hay una serie de discrepancias pero también es verdad que se actualizan los tramos y los importes máximos de la subvención en función del presupuesto disponible y también es verdad

de los establecimientos y la tasa de desempleo a uno de enero de dos mil dieciocho cosa que antes no había y creo que es de interés

y de problemas de desempleo tengamos fijadas también la cuestión de las ayudas en base a esas tasas de desempleo programa mec esta es una ayuda a la empresa comercial no a las asociaciones

y efectivamente se incorporan porcentajes nuevos de ayuda tres puntos adicionales por tener un plan de igualdad sí señora lópez de ocariz es necesario tener planes de igualdad

al comercio minorista cómo no se van a poder hacer si seguimos así igual borramos

los problemas o los temas sociales dos puntos adicionales si se realiza una inversión que aporte valor añadido carácter singular o que suponga una iniciativa innovadora en el tema de las divulgativas que usted es que eliminan el programa bueno

técnicas de comercio ni las propias asociaciones ni los comerciantes estiman conveniente mantener esta convocatoria y este programa porque ha quedado obsoleto en dos mil dieciséis de una cantidad de doscientos cincuenta mil euros tan solo desaprovecharon cien mil y en el programa de dos mil diecisiete amaitzen joan en los presupuestos de dos mil diecisiete de doscientos cincuenta mil tan solo se han utilizado

por lo tanto esta actividad este programa iba decayendo y la formación señora lópez de ocariz hay que trabajarla en clave de modernización de innovación de tecnología y de digitalización

que tiene el departamento del gobierno con los agentes con todos los agentes que trabajan en el sector comercial

suya la del gobierno vasco es la responsabilidad del dinero público de todos para que en colaboración con el sector privado podamos aprovechar sinergias y en definitiva impulsar y promover

sí tres líneas no lo digo porque es que al final

señor casanova para los socialistas y que quede claro y así constará en el diario de sesiones

encaje legal respeto institucional que para eso es una ley de instituciones

urbanística es de los ayuntamientos y competencia exclusivamente de ellos prudencia en el tema de la revisión

eguerdi on legebiltzarkideok el derecho a

ha sufrido una serie de reformas legales a partir del año dos mil dos que han acabado finalmente como una regulación de este derecho a la jubilación anticipada que se ha convertido

a la misma ya sean por causas no imputables a los propios trabajadores a través de despidos colectivos

ya sea también los casos de jubilación anticipada llamada voluntaria que también en muchos casos desde luego en nuestra opinión tampoco es realmente voluntaria las últimas modificaciones llevadas a cabo especialmente en los años dos mil doce y dos mil trece

a quienes teniendo largas vidas laborales se ven obligados a jubilarse antes de la edad ordinaria bien por no encontrar trabajo en sus últimos años de vida laboral bien porque consideran que

años de trabajo han llegado ya al final de su vida laboral

aun habiendo trabajado y cotizado durante largos años la iniciativa que presentamos hoy por lo tanto lo que propone es al gobierno central

dos medidas concretas que de aprobarse resolverían en buena medida

pensionistas afectados por este tipo de recortes

a las pensiones que les corresponden a quienes se jubilan anticipadamente tal y como permite la ley cuando estas personas tengan acreditados más de cuarenta años de cotización

supone que a las espaldas de estas trabajadoras y trabajadores hay una larga vida laboral y una larga vida de aportaciones al sistema público de pensiones

para que no se les penalice con una reducción de la pensión por jubilarse apenas un par de años antes de la edad considerada como edad ordinaria de manera especial además después de haberse elevado la edad ordinaria para la jubilación a través de una reforma llevada a cabo por el gobierno

una reforma a la que ya nos opusimos en su día desde izquierda unida y a la que seguimos y seguiremos oponiéndonos desde la coalición

además proponemos en la iniciativa que aquellas personas que teniendo menos de cuarenta años acreditados y a los que por lo tanto se les aplicase por el momento los coeficientes reductores

esas reducciones cuando lleguen a la edad ordinaria de jubilación para que a partir de ese momento cobren su pensión completa sin merma

se trata de una iniciativa por lo tanto con dos medidas concretas que pretenden revertir algunas de las medidas que han recortado y mermado las pensiones en los últimos años

a la ordinaria contemplada en la ley pensamos que no es de recibo que quienes se tienen que jubilar algunos años antes de la edad ordinaria que cada vez es más elevada debido a la reforma llevada a cabo por el partido socialista en el año dos mil doce

esa jubilación no es realmente voluntaria y cuando muchas de estas personas han cotizado durante muchísimos años y han aportado a nuestro sistema de reparto de las pensiones miles de trabajadoras y trabajadores

por no poder encontrar trabajo a los sesenta y tres años de edad habiendo agotado las prestaciones por desempleo

esa voluntariedad es por lo tanto en nuestra opinión bastante relativa en muchos casos por no decir que no es voluntaria en muchos de ellos

y también otros tantos de miles de trabajadoras y trabajadores se ven obligados a jubilarse anticipadamente de forma no voluntaria debido a que sufren despidos colectivos

ven recortada su pensión por esa razón algo a todas luces injusto y que no se resuelve con coeficientes de reducción más pequeños y que necesita en nuestra opinión al menos que cuando estas personas lleguen a la edad ordinaria de jubilación tengan su pensión integra sin aplicársele coeficientes

esta propuesta además que traemos al parlamento vasco procede de una reivindicación promovida por miles de afectados y afectadas en todo el estado y que ya ha sido aprobada

incluidos varios parlamentos autonómicos que han solicitado al gobierno del estado la aplicación de los cambios propuestos hoy en el parlamento vasco por nuestro grupo parlamentario

ha sido defendida por izquierda unida y por podemos en varios parlamentos autonómicos y ha contado con el respaldo en varios ámbitos del propio partido socialista

del estado es más el propio partido socialista la ha presentado y defendido en alguna institución como el parlamento andaluz donde encontró desde luego el respaldo tanto de izquierda unida como de podemos precisamente por eso yo me llevé una sorpresa partido nacionalista vasco y partido socialista presentaron una enmienda a la totalidad que excluía las dos medidas concretas que proponemos y planteaba una redacción generalista para abordar la cuestión pero sin medidas concretas una sorpresa

a favor de estas dos medidas en otras instituciones parecía un ejercicio de incoherencia

una transacción en la que recogiendo su enmienda generalista

pensaba que ese sería el acuerdo pero la verdad es que me encontré con una segunda sorpresa una contra propuesta en la que se incluían elementos nuevos como la elaboración

pero que se cepillaba buena parte de las medidas concretas que proponíamos no había acuerdo posible en esos términos porque solo proponemos en nuestra iniciativa dos medidas concretas sobre las que ya se han manifestado de manera positiva en otras ocasiones tanto partido nacionalista vasco como partido socialista

en parte los nuevos elementos que se nos proponían se recogiesen las dos medidas concretas

registrábamos en nuestra iniciativa original y de las que no nos podíamos descabalgar finalmente yo tengo que agradecer a ambos

esa transacción una transacción que en mi opinión no supone tanto en ser generosos sino que supone ser coherentes

a esta cámara por lo tanto desde mi grupo parlamentario estamos satisfechos porque la iniciativa que traemos a la cámara va a ser aprobada por una amplia mayoría

parlamentario de eh bildu que no presentó enmienda la va a respaldar y si es así vaya por delante nuestro agradecimiento de antemano tanto por no haber hecho enmienda

como por respaldar la transacción a la que finalmente hemos llegado desconozco lo que hará el partido popular pero al menos hasta ahora se han opuesto a estas medidas y he de suponer que hoy también lo van hacer y se van a oponer a no ser

hagan un ejercicio de oportunismo político y nos den su respaldo yo me imagino que no creo que no

evidentemente no nos van a respaldar bien quisiera expresar también que esta iniciativa pensamos que no puede quedarse en una declaración de intenciones y mucho menos en un brindis al sol y creemos que debe haber los elementos suficientes para que esto sea así y finalmente se ejecute con lo que aprobamos hoy interpelamos al nuevo gobierno socialista

que ha dicho defender cuando estaba en la posición hasta hace apenas semana y pico yo soy y tengo que reconocerlo de los que no tienen

no espero gran cosa de ese gobierno no creo que vaya a hacer los cambios políticos y económicos que necesita el estado en un momento tan delicado cuarenta años después de la constitución

lo digo con total honestidad ojalá me equivoque pero creo que no será así no solo por su débil respaldo parlamentario sino también por su programa político pero creo que al menos sí se le debe exigir coherencia con lo que ha estado defendiendo durante estos años

en madrid cuando nosotros registramos esta iniciativa gobernaba desde la mocloa el partido popular y a ellos iba dirigida por lo tanto la iniciativa

este pasado lunes de nuevo en la manifestación en bilbao las pensiones se defienden gobierne quien gobierne por lo tanto ahora la iniciativa se dirige al gobierno socialista

lo que aquí se propone porque ha dicho defenderlo durante los últimos años la nueva ministra de trabajo y seguridad social

ya que ella misma ha participado en las movilizaciones que pedían la eliminación de los coeficientes reductores para quienes se jubilan anticipadamente con más de cuarenta años cotizados yo he encontrado una foto en la que la ahora ministra se coloca detrás de una pancarta precisamente reivindicando aprobamos bien por lo tanto ahora esto está en sus manos está en sus manos poder llevar a la práctica esta reivindicación y por lo tanto

no les va a valer ningún tipo de justificación si no se aprueban estas medidas que hoy traemos nosotros al parlamento vasco por lo tanto

que la iniciativa que se aprueba hoy la transacción que se aprueba es un éxito

ni un éxito para ningún otro grupo parlamentario es un éxito para las y los afectados muchos de ellos organizados que han venido defendiendo esta reivindicación justa de un tiempo a esta parte algunos de ellos están hoy aquí también defendiendo esta reivindicación pero es un éxito

absoluto si el gobierno del partido socialista no lo cumple a nosotros nos tocará presionarle desde este parlamento una vez aprobamos esa iniciativa y pedirle coherencia veremos yo espero que lo cumplan nada más eskerrik asko

hoy recuperamos el debate sobre el sistema público de pensiones con un asunto que ha todos sin excepción se nos había pasado citar el pasado uno de marzo cuando alcanzamos

forzosas porque efectivamente no es que coincidamos con elkarrekin podemos sino que el grupo socialista presentó hace más de un año una proposición en el congreso de los diputados esta que está aquí que se vetó por parte del congreso del partido popular y que viene a recoger toda la casuística que se plantea en esta iniciativa por lo tanto yo entiendo también que el señor hernández quiera hacer un poquito de causa de partido verdad pero en fin quiero decirle que si le va bien a este gobierno

y el fracaso de este gobierno sería el fracaso de todos por lo tanto esto no solo depende de la iniciativa política del partido socialista que ya está registrada desde hace un año depende también del apoyo de todos aquellos que apoyaron la moción de censura y a la responsabilidad de todos ellos

ya se presentó esta iniciativa en el congreso hace más de un año una iniciativa que buscaba la recuperación de los derechos cercenados cuando el pp no solo gobernaba sino que abusaba de su mayoría absoluta como todos sabemos y muchísimos padeces el milagro económico de estos pasados años consistió

de los derechos de los más vulnerables el ahorro se convirtió en el mantra que justificaba cualquier decisión sin tener en cuenta

y las personas pensionistas sufrieron doblemente esas decisiones

de la salud a la población en situación administrativa irregular privó a muchos pensionistas de adquirir la medicación que necesitaban aquí en euskadi se adoptaron medidas que compensaran aquel desmán a los socialistas que hace seis años estábamos en estos escaños no se nos olvida que fue

de impedir con nuestras competencias ese recorte brutal a nuestro garantista sistema público de salud lo que provocó entre otras cosas que el pp se desentendiera de la estabilidad en euskadi hoy podemos decir que la iniciativa que adoptamos de exprimir nuestras competencias para paliar esa tropelía

es además un recorte de los que hay que revertir y después también a los pensionistas a partir del dos mil trece les tocó seguir pagando la factura de la crisis en las pensiones con aquel decreto legislativo que introdujo los factores de

en contra de lo previsto en el artículo cincuenta de la constitución también esto también el empobrecimiento de nueve millónes de personas de medio millón en euskadi pasa al primer plano de la agenda con este gobierno el ejecutivo saliente mareó la perdiz con el pacto de toledo simulando reuniones sin impulso que quedaron en el limbo

pero ese pacto con consensos básicos y duraderos es la herramienta que el gobierno actual se ha propuesto recuperar y que ya ha puesto en marcha atendiendo a las demandas de quienes cada lunes siguen reclamando una respuesta de eso hablamos mucho el uno de marzo alcanzando un gran acuerdo grande porque estábamos casi todos los grupos que son también una proyección de los acuerdos que podremos lograr en el congreso y grande por su extensión y detalle

a veces olvidamos a determinados colectivos o a determinadas casuísticas y esta probablemente es una de ellas es el caso de las personas que se ven forzadas a jubilarse de forma anticipada de un plumazo se vieron igualados por abajo con quienes tomaban la decisión libre de retirarse antes de la edad

los requisitos obligatorios para acceder al cien por ciento de la pensión en ese decreto legislativo de dos mil trece que se traspuso al texto refundido de dos mil quince

se aumentaron los coeficientes reductores a quienes anticipaban su jubilación y en este saco metieron también a quienes habían sido arrojados del mercado laboral y tuvieron que acogerse a ella obligatoriamente y estamos hablando de personas muchos miles que además de perder sus ingresos laborales veían cómo mermaba la cuantía que les habría correspondido si hubiesen accedido a la edad ordinaria pérdida que a su vez se consolidaba en el tiempo durante todo el tiempo de percibimiento de la pensión

sobre empobrecimiento a quien impuso aquel decreto la imprescindible necesidad de compensar el gasto que debía asumir la seguridad social por esa prestación adelantada

ni siquiera en los casos en los que como comentaba usted tenían acreditadas largas carreras de cotización que justificaba cobrar el cien por ciento de la base reguladora

a miles de trabajadores por eso mi grupo en la oposición en el congreso como ahora va a hacer desde el gobierno

de las personas que de forma involuntaria se ven obligadas a acceder anticipadamente a la jubilación y específicamente a quienes han acreditado largas carreras de cotización

de que estas medidas de reversión tienen consecuencias en el sistema de seguridad social que es preciso cuantificar es lo que planteamos ya hace tiempo en el congreso y lo que planteamos también aquí en esta enmienda compartiendo el objetivo último del proponente devolvamos el detalle al lugar del que no debió salir el pacto de toledo

para buscar las fuentes necesarias de ingresos que existen las pistas están

ya se sitúa este coste en el ámbito de las aportaciones de los presupuestos generales del estado a la seguridad social que probablemente sea uno de los recursos de los que tenga que dotarse el sistema público de pensiones en el futuro por tanto compartimos el cambio de regulación en las modalidades de acceso

porque no tienen en cuenta las formas de acceso ni los tiempos acreditados por el pensionista

entrar a lo concreto que es básicamente adecuar los coeficientes de reducción a las carreras de cotización y suprimir los coeficientes reductores

si se acredita una cotización que dé lugar a los derechos máximos y determinar también

para atender esta justa demanda y yo señor hernández sí tengo confianza en este gobierno y estoy seguro de que caminando juntos se conseguirán muchas cosas

legebiltzarkideok egun on denoi desde mil novecientos ochenta y nueve que me acerqué profesionalmente a él

y la ley general de seguridad social que es su esencia como una gran máquina repleta de tornillos tornillos que afectan a su funcionamiento tornillos

que están interrelacionados ajustar uno de ello repercute en todos los demás y supone en muchos casos tener que reajustarlos también en esta

que tienen un efecto muy potente e inmediato sobre su funcionamiento también hay tornillos más pequeños que aun teniendo menos efecto directo inmediato marcan la sincronía del sistema

la máquina tiene que funcionar persiguiendo un fin justo una sociedad con condiciones de vida dignas a través de prestaciones adecuadas desde el sistema de seguridad social la máquina tiene que estar perfectamente engrasada por el principio de solidaridad la máquina tiene que avanzar en coordinación con los objetivos sociales esenciales que hemos determinado y sin generar agravios y lo que nunca demos olvidar es que más allá de la máquina

elkarrekin podemos nos trae hoy esta iniciativa sobre las jubilaciones anticipadas donde a juicio del grupo proponente se producen algunas disfunciones del sistema o en el sistema

es la segunda iniciativa sobre el sistema de seguridad social como ya se ha dicho que tratamos en nuestro parlamento durante esta legislatura ambas sobre pensiones me gustaría recordar la primera

ustedes señor hernández nos trajeron un planteamiento de corrección de los principales parámetros del sistema

compartíamos gran parte del análisis referido a los retos a los que se enfrenta el sistema y a los tornillos que hay que mover también es cierto que teníamos acusadas diferencias en lo que hacía referencia a las concretas

a pesar de las diferencias conseguimos acordar acuerdo del uno de marzo fuimos capaces de cerrar un texto de siete puntos esenciales

principios derogación de la ley veintitrés barra dos mil trece

los referidos a los gastos del sistema derogar la reforma laboral y la inmediata transferencia del dieciocho punto dos del estatuto de gernika pero más allá de la importancia del texto del acuerdo

mayúscula a futuro para nosotros fue fundamental la metodología que utilizamos

han mantenido los gobiernos del estado en materias de seguridad social improvisación visión a corto y falta de acuerdo más allá de una exigua mayoría incluso alguna mayoría absoluta en sí como le decía yo al señor

en ese acuerdo del uno de marzo todos excepto el partido popular utilizamos otra metodología el común denominador y nosotros seguimos abogando por ella

y el partido nacionalista vasco nos planteamos de forma previa a aquel debate unas líneas básicas de actuación en el ámbito de la seguridad social modificar la metodología

y plantear nuevas y concretas soluciones y creo que funcionó

sienta en cierta manera unas bases comunes desde las que acometer la reforma del sistema de seguridad social

defenderá en el pacto de toledo una imagen respecto al sistema o mejor respecto a la ley general de seguridad social no es de recibo que la ley general de seguridad social

es esencial el consenso es la clave en seguridad social en pensiones hoy tratamos esta iniciativa en relación a la jubilación anticipada iniciativa también presentada en otros parlamentos como usted ha recordado castilla y león asturias cantabria la rioja aragón y canarias tornillo más pequeño quizás pueden pesar algunos aun así importantísimo importantísimo para la sincronía del sistema a nuestro juicio fundamentalmente porque hay que acabar con ese agravio e importantísimo cómo no para muchísimas personas trabajadoras

que coincidíamos pero me gustaría a modo de reconocimiento hacer una cita y abro comillas es una injusticia histórica que afecta a un importante colectivo de personas que ha sido objeto de preterición de derechos fundamentales y esenciales al margen de su voluntad particularmente el derecho al trabajo y a una cuantía determinada o predeterminada de pensión por actos de disposición en relación con los cuales ellos no han prestado ningún tipo de consentimiento

que usted también comentaba es una injusticia histórica que debemos corregir son palabras del diputado del partido nacionalista vasco en el congreso emilio olabarria pronunciadas el veintiuno de febrero de dos mil seis dos mil seis en defensa de esta

sí esta iniciativa no una iniciativa similar a esta parecida a esta comparable equiparable equivalentes semejante a esta no esta iniciativa señor hernández esta

su iniciativa no su de usted o de su portavoz en el parlamento de castilla león asturias cantabria la rioja aragón o canarias donde también se han presentado es en defensa de su las del señor olabarria nuestro grupo parlamentario

registró esta proposición no de ley el veintiséis de enero del dos mil cinco todas todas y cada una de las palabras ni una más

son nuestra exposición de motivos en el congreso la parte dispositiva cambia en lo referido exclusivamente al marco normativo real decreto legislativo

en la de ustedes doce años después un poco más de creatividad señor hernández sorpresa sorpresa la mía cuando leí esta iniciativa

en cualquier caso en cualquier caso para mí es importante avanzar seguir actuando para corregir esa injusticia histórica

tiene que servirnos para llegar más allá en terminar

hacia muchísimas personas trabajadoras cómo terminó aquella iniciativa

en el que efectivamente se diluía bastante el planteamiento que nosotros realizábamos en el dos mil cinco cómo me gustaría que termine

sin duda de otra manera dónde puede estar la diferencia de que termine de otra manera pues fundamentalmente en la metodología del consenso

creo que a todos nos ha dejado nuestro acuerdo de uno de marzo en concreto dónde

usted también le sorprendió de la recomendación once del pacto de toledo donde se trata el objetivo donde lo que se trata es el objetivo de restaurar una proporcionalidad adecuada entre el esfuerzo contributivo que se hizo como cotizante

que se percibirá como jubilado o jubilada nosotros

allí me alegro de haber firmado este acuerdo transaccional marca una evolución centrada en el consenso es una versión muy mejorada adaptada al tiempo actual

que si en dos mil cinco fue puntera hoy sin ninguna duda debemos adaptarla al actual escenario

muchas gracias señora presidenta señor hernández yo también estoy sorprendido

estoy sorprendido de que el partido socialista vote esto

y todavía más sorprendido de que usted vote esto y me voy a intentar explicar

ustedes todos lo que están planteando

de las jubilaciones voluntarias forzosas que es otro artículo estamos hablando de las voluntarias a mí como me da la gana me jubilo anticipadamente porque me da la gana este articulito que nos ha traído el señor hernández no el de los forzosos vale que por cierto la ministra

social fátima báñez a esos que ustedes decían que se jubilaban última hora se tenían que jubilar después de haber estado los últimos años en paro siendo mayores

de que esos señores puedan elegir los años que más les convenían para que su jubilación fuera a mejor todos ustedes votaron en contra y por eso no se aprobó o sea que no vengan aquí ahora de lagarteranas diciéndonos no se qué cosas señor hernández yo no sé ustedes en que parlamentos autonómicos han llevado esto

sí sé que lo han llevado al congreso de los diputados sí sé y además su iniciativa que es de dieciséis de marzo

yo tengo aquí el boletín oficial del congreso de los diputados proposición de ley presentada por el grupo parlamentario confederal de unidos podemos en marea creo que es su grupo y su partido creo que es el suyo no quiere que le diga lo que dice de su reforma

que no sabe lo que plantea su grupo y su partido en el congreso de los diputados que es donde son competentes sabe lo que plantean ustedes

nada de que con cuarenta años me jubilo y cobro la máxima

y nada de quitar los coeficientes correctores los modifican

un doce por ciento de disminución es lo que plantea elkarrekin podemos en el congreso de los diputados en una proposición de ley que se está tramitando hoy

la oportunidad de aprobar allí si quieren

lo que sea en esta propuesta que por supuesto elkarrekin podemos no ha planteado lo que se va a botar aquí si no todo lo contrario

quiere que se lo lea jubilación anticipada

la edad de sesenta y tres años el texto actual dice que se puede rebajar en dos la jubilación anticipada y dice en dos y no dice sesenta y tres porque usted aquí se carga

porque yo no sé si ustedes saben que en españa desde los cincuenta y dos años depende de qué profesión hasta los cincuenta y cinco los sesenta la gente se puede

no prejubilar voluntariamente y por eso la ley dice dos años antes porque es voluntario y desde luego a mí sí me parece justo que si alguien decide voluntariamente jubilarse antes y deja de cotizar evidentemente que cobre menos pensión

es lo que nos están planteando todos ustedes aquí que es que saben lo que estaban planteando de verdad que se rebaje la edad de jubilación en dos años a los sesenta y tres eso es lo que ponen

porque al final vas a cobrar lo mismo si vas a cobrar lo mismo

sin haber cotizado dos años eso es lo que están haciendo por cierto también me sorprende que el partido socialista que es el que incrementó la edad de jubilación

que voluntariamente puedo jubilarme a los sesenta y tres eso es lo que están planteando de verdad que van a aprobar esto ustedes en el pacto de toledo oiga a mí igual hasta me viene bien no lo sé no lo sé

tan fenómenos y tan guays y lo que tengo que decir es que la enmienda transaccional es absolutamente patética

ustedes deciden lo que hay que hacer y después deciden pedir un estudio

primero el pacto de toledo si necesito un estudio y luego se acuerda en función de eso las medidas

y por cierto por cierto solicitan a la autoridad independiente de responsabilidad fiscal un estudio sobre la situación actual de las jubilaciones anticipadas yo no sé si saben cómo funciona

que no tienen competencia no tenemos competencia para pedirlo y segundo que cobran dinero por los estudios que hacen cobran hay que pagarles

está usted dispuesto a que desde el país vasco paguemos este estudio que según ustedes hace falta porque según ustedes no está hecho

hace falta y luego se lo mandamos al pacto de toledo oiga es

oiga nosotros estamos abiertos perfectamente señor hernández no sabe qué bien se vive contra el gobierno

que va a solucionar los problemas de todo el mundo nosotros nos abstendremos

es que en el sistema de pensiones estatal se está dando una paradoja por un lado la normativa está encaminada a retrasar la edad de jubilación hasta los sesenta y siete años y se han endurecido las condiciones para acceder a la jubilación anticipada pero a la vez la cantidad de personas que acceden a esta que acceden a la jubilación anticipada ha ido incrementándose año tras año excepto en el ejercicio dos mil diecisiete que bajó levemente

dos mil dieciocho pues va a seguir la misma senda una parte de estos jubilados como ya se ha indicado

pero no es menos cierto que otros y otras lo son como consecuencia del desempleo al que les han abocado las últimas reformas laborales curioso

de las últimas reformas laborales sobre el sistema de pensiones estatal generalmente estas son personas con una larga carrera de cotización como se ha indicado y la verdad es que según los últimos datos a los que he podido acceder de febrero del dieciocho

algo superior a la pensión a la que acceden aquellos que se retiran con la edad de jubilación de sesenta y cinco años y cinco meses alrededor de mil ciento veinticinco euros de media también es verdad generalmente a estas pensiones a estas jubilaciones anticipadas por voluntad propia pues no accede cualquiera sino generalmente aquellos que han tenido unos trabajos con unos sueldos que les han permitido hacer

a ello y esto ocurre a pesar de que la pensión de jubilación anticipada se recorta como se ha dicho con esos denominados coeficientes penalizadores que suponen

del seis por ciento por cada año de anticipación respecto a la edad legal de jubilación y en concreto casi siete

insisto para el resto de su vida por el efecto de estos coeficientes reductores y en términos generales la verdad

se vieron aminoradas en cierta manera por estos ajustes por lo tanto estamos una vez más

por las diferentes reformas del sistema de pensiones encaminada una tras otra a presar los derechos y los y las trabajadoras y por supuesto

no son una excepción ya que las últimas reformas también han incidido en ellas como se ha indicado y consecuencia de ellos es también el incremento de las jubilaciones

como comprenderán a mí me sorprende y me sorprende mucho isiltasuna

mucho la presencia de la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal en esta propuesta y lo saben los firmantes porque con algunos de ellos lo he comentado me chirría no es

que sea santo de mi devoción no puede ser santo de mi devoción una autoridad que ha venido y que surgió para ser garante

del artículo ciento treinta y cinco de la constitución por lo tanto no puede ser santo de mi devoción es que esta misma autoridad

dice que su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo ciento treinta y cinco de la constitución mediante la evaluación continua ciclo presupuestario del ordenamiento público

pues no es que yo ni eh bildu consideremos a la autoridad independiente de la responsabilidad fiscal el órgano idóneo para hacer un informe sobre las jubilaciones anticipadas incluso me atrevería a decir casi

de la ciudadanía sinceramente pero bueno son ustedes los que han firmado la transaccional

sí que es verdad que creo que ha quedado ciertamente descompensada con esa última introducción del informe y demás la iniciativa inicial del señor hernández

que se habla de medidas concretas y no sé por qué luego ustedes han optado

si ustedes han considerado oportuno no voy a ser yo la que les enmiende la plana

una dos veces o tres veces el famoso acuerdo del uno de marzo que este también vamos a tener que ponerle una placa como otro acuerdo que prefiero no recordar pero sí quiero que ya que estamos hablando de pensiones y de que el nuevo gobierno del estado

en aquel acuerdo también se hablaba de la transferencia de la gestión económica de la seguridad social y señor pastor

escasos días antes de que el señor sánchez accediera a la presidencia del gobierno del estado español el grupo del partido socialista obrero español votó en contra de eso
en el congreso de los diputados pregúntele por qué fue así señor pastor eskerrik asko pinedo

a abstener ya veo que sí que se vive bien en la oposición como usted dice señor damborenea y eso le permite a usted abstenerse ante una iniciativa que si la hubiéramos traído hace dos semanas

hubiera votado en contra en cualquier caso yo voy a trasladarle que yo espero que ustedes estén en la oposición durante mucho tiempo

en los compañeros del partido socialista yo no voy a tirar de hemeroteca sobre quién registró la primera iniciativa sobre esta cuestión si el señor aiartza dice que los primeros en registrarla fue el partido nacionalista vasco a mí me parece estupendo no tengo ningún problema si yo estoy de acuerdo con el contenido yo defiendo

lo que sí sé es que mi organización política izquierda unida ha mantenido una posición coherente también desde hace muchos años sobre esta cuestión y que es verdad que en algunos momentos habremos podido registrar iniciativas más ambiciosas y en otros momentos

ambiciosas como en lo que se refiere a esto concreto no a otras cuestiones se está tramitando en estos momentos en el congreso de los diputados

traía mi grupo al parlamento vasco no era una iniciativa nuestra sino que venía de la presión

trabajadores que se han venido moviendo en el conjunto del estado para que los grupos políticos defendamos sus reivindicaciones si vemos que estamos de acuerdo con ellas y yo por lo tanto no vengo a autoconcedernos ninguna medalla

sobre la iniciativa original que viene promovida precisamente por las y los trabajadores afectados y sí se hace de nuevo referencia al acuerdo del uno de marzo no yo tampoco creo que sea para ponerlo

porque recoge una serie de medidas concretas muy importantes que

el partido socialista impulse desde el gobierno y yo creo que es verdad que necesitará respaldos parlamentarios y desde luego en esas medidas concretas estoy seguro que las tendrá

de equo de podemos y de izquierda unida pero le corresponde al gobierno desde luego poner el impulso si el gobierno no está decidido a llevarlas a delante no saldrán

al actual gobierno y bien nosotros estamos de acuerdo con que muchas de estas cuestiones se tienen que hacer con metodologías de diálogo y de consenso y el pacto de toledo puede ser un buen sitio o no pero puede ser un buen sitio efectivamente ahora yo

si el partido popular se ha permitido el lujo de aprobar reformas sobre las pensiones pasándose como ya he dicho más de una vez

yo creo que cuando las fuerzas que defendemos cambios en el sistema de modelos

como las que aprobamos aquel uno de marzo tenemos que impulsarlas y tenemos que sacarlas adelante por encima si hace falta del pacto de toledo esa es mi opinión porque creo que es absolutamente necesario revertir

viviendo en los últimos años sobre el sistema de pensiones y también y había referencia en mi anterior intervención brevemente a ello lo relativo a la edad de jubilación que salió adelante

con el acuerdo de los sindicatos cierto con el acuerdo de los

pero que nosotros desde luego estuvimos en contra y seguiremos estando en contra

también con cómo luego se han aplicado medidas como estas y las modificaciones que ha habido

reductores por lo tanto sí el uno de marzo nos dejamos lo que hoy ponemos sobre la mesa nosotros registramos por eso creo que fue el dieciséis de marzo o por ahí esta iniciativa para completarla

original nosotros hemos incluido en la transacción la referencia al informe que tendría que hacer la autoridad fiscal no porque estemos de acuerdo con esa autoridad fiscal como también ha expresado la señora sino porque es el planteamiento que nos hacían y era la opción para llegar a un acuerdo así que por nuestra parte que hagan un informe el que quieran que nosotros lo criticaremos pero precisamente por eso yo he dicho antes que a mí me sorprendió la enmienda del partido nacionalista vasco y partido socialista

con que nos la hubiesen votado a favor hubiera sido suficiente eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

bien como veo que se genera cierta inquietud por una parte en el proponente y por otra parte en el señor damborenea primero una afirmación lo que vamos a aprobar hoy está muy bien

es lo que se apruebe en el congreso de los diputados a efectos de lo que estamos hablando que es del sistema público de pensiones otros sé que tienen otro modelo irrealizable pero que defienden nosotros no

respecto a lo que estamos hablando hoy y dice literalmente para tranquilidad del señor damborenea

el congreso de los diputados considera necesaria la modificación de la actual regulación de las modalidades de acceso anticipada a la edad de jubilación en cuanto suponen una minoración muy importante de la cuantía de la pensión a percibir por el interesado que no tiene en cuenta en la medida necesaria

así como los tiempos de cotización acreditados por el pensionista dos en tal sentido insta al gobierno para que solicite de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal esto que la señora

un estudio sobre el actual situación de las jubilaciones anticipadas la forma de acceso de las misma

y otras variables que permitan cuantificar el impacto de la adopción de las siguientes medidas en su aplicación en los supuestos en los que el acceso a la jubilación

de la ley general de la seguridad social cuando en este último caso el acceso a la jubilación haya venido precedido por un despido o cualquier otra forma de extinción de la relación laboral

en ese sentido en primer lugar adecuar la determinación de los coeficientes de reducción de la pensión de jubilación a las carreras de cotización que presenten las personas que pretenden acceder de forma anticipada la jubilación b la supresión de los coeficientes reductores aplicados con ocasión del acceso anticipada a la jubilación

cuando en el momento de causar la pensión se acredite un periodo de cotización que dé lugar a los derechos máximos de la pensión y punto tres

el gobierno remitirá al mismo a la comisión de seguimiento y evaluación

y es verdad que no es el bálsamo de fierabrás el pacto de toledo se constituyó como un pacto político para evitar que los acuerdos que en ese sentido tomase un gobierno fuesen cambiados por el gobierno siguiente

y esa debiera de seguir siendo pero tampoco lo sacralizamos en cualquier caso nos parece un instrumento importante bien

y el debate parlamentario oportuno procederá a elevar a la comisión de empleo y seguridad social del congreso de los diputados el informe correspondiente en el que se contenga las propuestas oportunas en orden a la mejora de la cobertura social

para su tramitación parlamentaria partido socialista obrero español esto es lo que realmente va a cambiar las cosas lo que hagamos aquí está muy bien como ayuda pero esto es lo que va a cambiar cuando se vuelque en el boletín oficial y en el supuesto a usted ya se le irán quitando los recelos y las desconfianzas todo es cuestión de tiempo pero esto es lo importante

y esta es la propuesta del partido socialista obrero español y del gobierno eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak sí simplemente una apreciación como me queda un poco de tiempo

respecto a la propuesta que hicieron ustedes sobre el traspaso de las competencias

nosotros respetamos defendemos y lo hemos defendido allá en madrid el traspaso de la gestión del régimen económico de la seguridad social de acuerdo a lo que dice la disposición que no es lo que decía esa enmienda que usted hace referencia tenía otra literatura un poquito más tramposa que hablaba de otras cosas de las que no habla

vender duros a cuatro pesetas porque eso está muy visto eskerrik asko pastor jauna euskal

eskerrik asko berriro tenemos acuerdo firmado y además hasta el señor damborenea

el acuerdo del uno de marzo efectivamente más allá de los siete puntos

hoy del acuerdo del uno de marzo es la metodología el ochenta y ocho por ciento de esta cámara apoyó ese acuerdo después del trabajo

el pacto de toledo pacto de toledo yo no soy un fan del pacto de toledo pero siempre he pensado siempre he defendido

una herramienta de previsión una herramienta de prever de estudiar

y plantear soluciones a esos retos antes de que nos demos de contra esos problemas no que es que lo que ha ocurrido

soy partidario de esa herramienta el nombre ya es otra cosa efectivamente señor hernández

pero no es nuestro nosotros recogemos ese texto como usted dice de las personas que nos hacen partícipes de sus momentos de zozobra en un

como el de la jubilación y me dice por qué no la votaron sin más sí bueno

doce años hacen que hayamos tenido experiencia que era lo que le comentaba anteriormente y que podamos hacer planteamientos estratégicos

estratégicos mejores le comentaba el señor pastor cómo está viva esa cuestión en el congreso de los diputados también hay otra hay

proposición no de ley de compromís firmada por el señor ignasi candela que efectivamente recoge la parte dispositiva

candela es mucho más creativo que ustedes en la exposición de motivos muchísimo más una exposición de motivos excelente a mi juicio

en encauzar estos dos planteamientos que es lo que aquí hemos hecho

el señor damborenea nos decía pues eso a pesar de que ha avanzado en los últimos días y se ha acercado a estas posiciones

de vivir mejor nos decía y vive usted ahora mejor y nos plantea la abstención estupendo algo ya hemos conseguido algo ya ha conseguido usted con esta iniciativa

a parte de la inutilidad del texto que nosotros planteábamos no no es así

se hace es determinación del objeto de las medidas determinación de las medidas en el primer punto se determinan las medidas

esas posibles en muchos casos deficiencias que son deficiencias eso hace el primer

de nuestro texto de acuerdo en el segundo punto se insta y yo firmo ese acuerdo insto yo también hago parte de él insto al gobierno del estado

sea yo no voy a pagar ese estudio es el gobierno léalo léalo

el que solicita el estudio y que en el tercer punto que el gobierno del estado remita al pacto de toledo el correspondiente estudio creo

y marca una pauta o puede marcar una pauta para que esas dos líneas confluyan en el pacto de toledo eskerrik asko

creo que ustedes no se creen que tienen razón porque siguen haciendo trampa todos

señora pinedo no estamos hablando de desempleo

jubilación voluntaria regulada en el artículo doscientos ocho y hay un artículo doscientos siete señor pastor que es el que habla de jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador

están haciendo trampa lo cual significa que no se creen lo que han acordado

y dejen de engañar vamos a ver

nadie se jubila anticipadamente dos años antes es lo máximo que permite la ley porque pueden venir tiempos peores primero porque dentro de esos dos años

me puede jubilar dos años antes o

o dentro de un año o dentro de seis meses o sea nadie lo hace porque las perspectivas sean mejores o peores porque es voluntario lo que pasa es que cuanto antes lo haces evidentemente vas a cobrar menos pensión que el coeficiente reductor te penaliza más te penaliza más que por cierto es lógico

se vive mejor que es distinto porque nosotros somos responsables hasta en la oposición y por eso nos vamos a abstener y no

si fuéramos como ustedes estaríamos diciendo aquí ala venga vamos a votar y por qué solo

a los sesenta y tres años oiga a los sesenta y con la máxima o qué pasa por qué somos tan cutres pero somos responsables hasta en la oposición y hombre que me venga usted diciendo

es una forma de hacer política pero extraña nosotros en fin recogemos iniciativas de gente que nos la trae a la calle si nos la creemos

pero la presentamos aquí la presentamos en el congreso y la presentamos la misma en todas partes y eso es coherencia

traer una iniciativa aquí y al mes siguiente en el congreso plantean lo contario

pues ya vemos en fin la naturaleza de este acuerdo y hasta donde va ir de lejos señor pastor

lo que vale es lo que se apruebe en el congreso efectivamente vamos a ver lo que aprueban ustedes en el congreso de los diputados y no me haga trampa con la pnl con su propuesta del partido socialista que han hecho para las jubilaciones anticipadas forzosas y por eso hablaba de despidos por eso hablaba de despidos y aquí no estamos hablando de esas hablamos de las voluntarias

de porque me da la gana no me haga trampa aquí todo el mundo

es que algo no le cuadra a ninguno de ustedes incluido evidentemente

porque ustedes lo citan en su transacción y dicen se remita al pacto de toledo pues oiga se remiten al pacto de toledo me parece muy bien

también alguien ha dicho que el partido popular se pasó por no sé dónde el pacto de toledo quiero recordar que fue el señor rodríguez zapatero si yo no recuerdo mal el que congeló las pensiones

digo por comentar y que en estos últimos cinco años ningún grupo de esta cámara ha estado dispuesto a llegar a ningún tipo de consenso en materia de seguridad social ni siquiera cuando la ministra fátima báñez a esos forzosos

cuando propuso cambiar la legislación para que pudieran elegir los mejores años los que más les convenían votaron todos en contra

aquí parece que todo el mundo está discutiendo a ver de quién es el hijo

a mí personalmente me importa más bien poco a mí lo que me importa es aquellas personas que se han visto

sí claro porque me parece mal lo que se está haciendo y que usted me venga aquí a decir que el partido popular por lo menos puso sobre la mesa algo para intentar solucionar la situación

a la jubilación anticipada forzosa por haber sido expulsadas del mercado de trabajo como si ustedes no hubieran tenido nada que ver en esa expulsión del mercado de trabajo ya me parece

y ya siguiendo con el tema yo ya no voy a seguir mucho más porque

levantar el ala señor pastor que usted al final ha tenido que volver para contestarme porque le ha podido

el instinto mire boletín del congreso de los diputados y lo propuesto por eh bildu era

de todas las competencias pendientes relativas a la seguridad social

y dice referentes al desarrollo legislativo a la ejecución de la legislación básica del estado y a la gestión del régimen económico de la seguridad social esto es lo que viene en el estatuto de autonomía y esto

junto al partido popular y a los señores y señoras de ciudadanos así que a lo hecho pecho señor eskerrik asko pinedo